de voto ah contra vosotros vale eskerrik asko mahaiburu andrea egun on

agradecer también el trabajo anterior de legislatura anterior para que esta proposición pueda

de hoy de nuestra compañera edurne garcía y también de nuestro compañero

esta proposición de ley y también

agradecer el trabajo de nuestro equipo técnico y en este caso de la propulsión de ley a lorena vicioso a laura yanguas y también a miguel

sin ellos y sin ellas este tipo de proposiciones no podría salir adelante y además también agradecer a las entidades que nos han ayudado y sobre todo que están luchando por aprobar mayores regulaciones en materia del juego como son eragin que está presente aquí en este pleno o asociaciones como ekintza

por vuestro empeño en demostrar que el juego es un negocio que genera además un problema social y económico que hay que regular con fuerza para combatir sus efectos nocivos sí que me gustaría situar al principio el tema sí que valoramos y así lo hemos dicho en reiteradas ocasiones el trabajo del observatorio vasco

ha tenido su primer contacto con el juego entre los dieciocho y los treinta y cuatro lo cual puede parecer normal pero

años tenemos el triste récord de ser el territorio euskadi que más gasta por jugador en el estado español treinta y nueve euros en gipuzkoa veinticuatro en araba y veintidós en bizkaia cuando la media estatal es de ocho

pero el dieciocho casi dieciocho millónes de euros fueron en el juego presencial según el departamento de salud cuarenta y tres mil personas en euskadi son las que presentan un trastorno de juego patológico y que hasta un cinco por ciento de la población joven se enfrenta

su auge no es fruto de la casualidad sino del fracaso de un modelo de sociedad

e individualista que no está ofreciendo alternativas de ocio sanas baratas y accesibles a la juventud y por eso hemos visto y no por otra razón hemos visto crecer la presencia de casas de apuestas en nuestras ciudades y en los barrios obreros de las mismas y en nuestros pueblos y esto lo vimos además también con toda su crudeza en la pandemia cuando en el primer estado de alarma el gobierno de españa prohibió prácticamente la publicidad del juego y en cuanto

las empresas voraces del juego inundaron inundaron segundo tras segundo todos los medios de comunicación con su publicidad abusiva y

en euskadi con empresas muy concretas y muy particulares apustu

adierazi behar dugu el sector del juego generó en euskadi casi el uno por ciento o alrededor del uno por ciento

dos datos en dos mil trece el beneficio de estas empresas del juego fue de dieciséis millónes de euros en dos mil dieciséis de cuarenta y dos millónes de euros y en dos mil diecinueve aún mayor y además por cierto generalmente

empleo nada más lejos de nuestra intención en ese tiempo que subió de dos mil trece de dieciséis millónes a cuarenta y dos millónes se crearon treinta y dos empleos netos en el sector del juego en euskadi decía que euskadi además tiene una particularidad respecto al resto del estado y es que el juego

se concentran dos mil cien máquinas en tres empresas muy concretas

son kirolbet y son garaipen codere creo que les sonarán a todos y a todas

deportivos que por cierto gracias a la labor de unidas podemos en el gobierno de españa a partir

estarán prohibidas y solo hay que ver también los accionistas y las accionistas de estas empresas para entender algunas cosas

frente a esta realidad elkarrekin podemos izquierda unidatik

en el gobierno de españa y el trabajo del ministerio de consumo se aprobó como saben el real decreto de publicidad del juego además de otras medidas que han supuesto las primeras normas en materia de publicidad y un poco de coto a la ley de la selva que reinaba hasta ese

estas subvenciones y estas ayudas fueron lo sabemos

muchas veces con mucha soledad para tratar los problemas con la

que se incrementara el presupuesto para poder a hacerlo estas son algunas de las medidas que hemos que hemos presentado pero medida más importante pensamos que es esta proposición de ley para modificar la ley del juego en euskadi de mil novecientos noventa y uno

y más seguridad jurídica que la que presentamos en la legislatura pasada y sobre eso el gobierno vasco no ha dicho nada por tanto

seguridad jurídica algunas de las modificaciones que hemos introducido

salud a través del juego nos quieren vender a la juventud de la clase trabajadora cada vez en una peor situación económica la falsa ilusión

rápido a través del juego para ganar millónes con lo poco que tenemos por eso hablamos de calidad

a la misma porque es un dinero que sale del bolsillo de la clase trabajadora y va al bolsillo y a los beneficios de estas privadas y como siempre la banca siempre gana el ejemplo de bilbao cincuenta casas de apuestas y salones de juego yo creo que todos ustedes conocerán

no excesivamente extensa pero sí muy poblada y con mucho movimiento en zabalburu hay cuatro salones de juego dos casas de apuestas

metros además siguiendo hablando de bilbao que podríamos hablar de cualquier otra ciudad del país vasco treinta y dos centros escolares en bilbao

metros de su entrada el gobierno nos dice que según que va a realizar un que está realizando un estudio poblacional para dimensionar en base a las circunstancias socioeconómicas la presencia de las casas de apuestas y los salones de juego pero ese estudio si luego no se establece una limitación

bastante limitados proponemos la distancia mínima de quinientos metros

hori ezartzea hay un debate hay un debate abierto y un debate jurídico además muy interesante sobre

qué medidas se tienen que tomar pues bien la no toma en consideración de esta proposición de ley va

no lo vamos a saber porque este parlamento no va a poder decir nada sobre eso

ciento cincuenta metros del colegio san ignacio hay un bingo y quince metros

también tenemos otro salón de apuestas además en nuestra proposición de ley lo que proponemos también es regular la publicidad estática del juego

y equipararlo a la publicidad del alcohol y del tabaco

proponemos limitar el marco horario de apertura y de cierre de los locales de juego no solo del cierre de los locales de juego porque tampoco podemos aceptar que estos locales abran con unos horarios excesivamente pronto la mañana porque sabemos los efectos que tiene proponemos por tanto en la proposición de ley que el horario comprendido sea entre las doce y una

del país vasco y al no estar interconectados pues el fin de semana evidentemente cuando se acabe la pandemia puede ir cualquier persona que esté en el registro

y poder jugar y todos sabemos lo que supone el paso que se da cuando se va y se inscriben las personas en el registro de autoprohibidos y el

si no funciona de la manera que todos y todas seguramente deseamos baita ere eskatzen duguna da ikuskapenak indartzea porque es una herramienta muy valiosa pero

se redujo también el número de inspecciones baita ere el control de acceso

de acceso a todos los establecimientos de juego y a las modalidades de juego electrónico

las modalidades del juego incluidas también las máquinas situadas en los establecimientos de hostelería y que están conectadas además a la red no es normal que para el juego online los usuarios se tengan que identificar con su

y su tarjeta de crédito con todas las trampas que evidentemente puede haber porque

que está conectado también un sistema informático que está conectado una red de una empresa particular el juego sea absolutamente

lo que proponemos es que en las máquinas de kirolbet de reta de codere se tenga que poner un sistema interconectado de identificación y además comprobar

dentro de las medidas destacadas de la proposición de ley la creación de un fondo específico para la prevención y tratamiento de la adicción al juego de azar que me adelanto ha cambiado mucho sobre lo que habíamos escrito en la proposición de ley de la legislatura anterior y por tanto tampoco en el

a la contrariedad de este fondo bueno por lo que sabemos y según lo que hemos leído

algunas conversaciones que hemos tenido los grupos que apoyan al gobierno el propio gobierno no está dispuesto a que este parlamento discuta escuche enmiende e intente generar un gran

en el que sobre el papel sobre las declaraciones todos casi todos estamos de acuerdo el criterio desfavorable a la toma en consideración de esta ley aunque con alguna línea más de lo habitual

muy vagos muy poco jurídicos y lo único que

porque yo no tengo las claves tengo que pensar que es por la mayoría absoluta tengo que pensar que el partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra engañaron a mi grupo parlamentario sobre el papel que está escrito en la legislatura

tengo que pensar que se están defendiendo intereses que no se están explicitando en los debates que estábamos teniendo lo dejó a la consideración del pleno

luego nos dice que el gobierno de españa ha hecho

vía decreto intentando poner un argumento jurídico a una crítica política a la persona que está hablando porque pertenece a la formación del de consumo tampoco me parece un argumento jurídico muy potente el

en españa vía decreto se ha desarrollado una ley del año dos mil once en aspectos muy concretos en dos artículos concretos que estamos abordando pero aquí lo que estamos abordando es la reforma de una ley de mil novecientos noventa y uno de hace treinta años eso es lo que estamos haciendo

cosas y habrá cosas que seguramente habrá elementos habrá debates que quizás en la ponencia se pudieran quedar luego fuera de esta proposición de ley

etcétera claro pero no lo vamos a saber porque este parlamento no va a debatir sobre este tema

por lo menos en una ponencia de ley a colectivos como eragin como los colectivos de prevención de la ludopatía a las empresas por supuesto

de ley no vamos a negociar no vamos a consensuar no vamos a aprobar la mejor normativa que pudiéramos aprobar entre todos para proteger a las personas vulnerables a la juventud y a la clase trabajadora de los efectos nocivos

juego eso no va a pasar porque la proposición de ley no se va a tramitar señores y señoras disfruten de la mayoría absoluta porque ni este país es suyo

jolasaldietan joateko seguro que todas hemos comprendido que la realidad actual en cuanto a apuestas juegos o ludopatías poco o nada tiene que ver

en torno a comportamientos abusivos juego patológico adicciones sin sustancia pues habrá que hacerlo desde luego acorde a los tiempos pues precisamente la ley que regula el juego es del año mil novecientos noventa y uno como ya ha dicho el señor martínez de hace treinta años

problema serio con el juego ni siquiera habían nacido

principal la que regula esa ley está llena de telarañas la exposición de motivos de esa ley está absolutamente desfasada porque el enfoque

como parte del entramado económico los locales donde se practica el juego se limitan a bingos y casinos se obvian las apuestas digitales porque claro entonces

y en la parte sancionadora para que se hagan una idea las multas se cuantifican

gaude el juego patológico las adiciones sin sustancia adicciones comportamentales llamémosles como queramos siguen siendo una adicción

pero una adicción y las consecuencias para estas personas enfermas son iguales que las adicciones con sustancia hay dependencia hay pérdida

en la vida cotidiana de estas personas y de las que les rodean en muchas ocasiones en su ámbito educativo y en el laboral el juego con dinero

es más frecuente entre jóvenes de entre veinticinco y treinta y cinco años pero no no nos equivoquemos no son ni las únicas ni los únicos

no conoce edades por otra parte la pandemia ya sabemos que no nos ha traído nada bueno esto ya lo sabemos pero es que en este ámbito también ha tenido su incidencia la covid diecinueve ha incrementado las adicciones al alcohol y a los juegos

y angustia ha provocado que aumenten los casos de adicciones fácilmente de consumir en el hogar y en soledad y la pregunta que hay que hacerse es si realmente las conductas abusivas en el juego son una adicción porque si es así no solamente tienen cabida su departamento señor erkoreka gure aburuz arazo honek erantzun sendo

muchas veces en esta cámara también los pedimos pero como hemos dicho antes esto necesita algo más que el papel nos interesan los resultados que arrojan y las medidas

porque hicieron un buen trabajo que no negamos que en su día no fuese necesaria y valiosa pero es que necesita una actualización urgente desde la primera página

una larga lista de acciones e intenciones que se han puesto en marcha pero aun así pues la adicción a estas drogas sin sustancia no ha descendido más bien todo lo contrario

muchas gracias señora presidenta miembros del gobierno que quedan aquí de guardia señor vicelehendakari señorías
bien en primer lugar señor martínez zatón yo le agradezco que traiga este debate a esta cámara porque ciertamente me parece un tema

y tiene que ser analizado y yo creo que la cámara esta cámara la cámara vasca es el lugar ideal para discutir este tipo de iniciativas así como medidas de impulso político también

yo creo que es un debate que merece que lo traigamos aquí que lo reflexionemos porque además el tema de la regulación del juego es un tema complejo donde evidentemente hay intereses e intereses generales en juego

hay que poner de acuerdo la posición de nuestro grupo a pesar de que podemos compartir y compartimos y comparto además muy personalmente

es negativa y es negativa porque sí creemos que en este ámbito en este sector el instrumento jurídico

respuesta a la que luego me referiré sí que creemos que en este sector

es el mejor instrumento jurídico para regular y además le daré razones

en el ámbito este del juego la verdad es que en su propuesta y en la actuación y en la regulación del gobierno

que teniendo parte de razón no son del todo exactas

en todos sus aspectos se compara con eso con una enfermedad tal cual es algo negativo y por tanto es algo

y en el caso del gobierno pues el juego es una actividad muy peligrosa que tiene que estar muy controlada y ya la controlamos además como saben aquí el ámbito del juego depende del departamento de seguridad y depende de una dirección que está adscrita a seguridad cuando en otras comunidades autónomas

como ustedes saben pues no está en el ámbito de seguridad e interior puede ir basculando pero en otras comunidades autónomas normalmente la parte autonómica suele estar en el ámbito de consumo economía

en el ámbito del juego lo que creemos que tiene que haber es transparencia

transparencia en la situación y todo lo que implica el juego y sobre todo una transparencia necesaria para una concienciación de la ciudadanía de las personas afectadas de sus entornos y también de los padres que educan y que forman a sus hijos en el tema de la regulación del sector del juego que como

ha sido desarrollada recientemente a través de un decreto del gobierno de españa

de un miembro creo que además directamente de su partido pero sobre esto

un informe de propuesta normativa de la entonces comisión nacional de la competencia en la que efectivamente se establecía que la regulación del sector del juego tiene que acomodar y supone un duro un difícil ejercicio de acomodación de distintos intereses generales la salud pública que la han citado ustedes pero no solamente la salud pública sino también la lucha contra el fraude fiscal que me ha extrañado que no lo hayan sacado en su propuesta sí que hacen una propuesta de subir impuestos en un sector determinado

y la prevención de actividades delictivas junto con un derecho que parece que se nos ha olvidado pero que es un derecho gracias al cual luego se pueden recaudar impuestos y luego se puede financiar nuestro estado social que es la libertad de empresa que es la libertad también de empresa los intereses generales que la regulación del sector del juego tiene que armonizar esos son los intereses que efectivamente hay que armonizar

me ha llamado la atención que ha hablado usted del juego y tal

es evidente es evidente que dentro de lo que es esta situación pues hay personas

antes la señora blanco evidentemente estas personas merecen pues todo el apoyo

y además hay que adoptar medidas como ahora diré también para evitar que este tipo de situaciones se produzcan

cuando usted nos propone una regulación que es igual o menos restrictiva de la que tiene por ejemplo la sociedad neoliberal según usted por excelencia que es estados unidos usted sabe que en estados unidos

está tremendamente vamos reguladísimo es decir para abrir un casino falta una ley como poco

una concesión administrativa y además está prohibido en la mayoría de los estados

cuál es la posición mire el criterio que utilizó y que explicó

un departamento tenía un departamento de estudios con gente muy preparada

donde decía que efectivamente aquí hay una situación y un problema de salud pública que hay que tener en cuenta hay que regular algunas cuestiones pero sobre todo también hay que permitir

la libertad de establecer también un negocio una actividad económica en la que pues también se exista ese derecho oiga y también la libertad de las personas que quieren también recurrir al juego

la propuesta que hacen ustedes de hecho ya de por sí yo creo aunque insisto que le reconozco todo el trabajo y le reconozco además la pasión

y yo creo que es además digno de reconocer en este parlamento yo creo que nace en parte caducada incluso para los propios objetivos que ustedes dicen defender porque

hoy día la principal cuestión su propuesta de ley está esencialmente dirigida a lo que es el juego presencial cuando hoy día quizá la principal cuestión es el juego online el

ya no es ponerle puertas al campo ya es ponerle puertas al ciberespacio y esto evidentemente ya que hace falta una armonización y una coordinación entre las regulaciones nacional europea por cierto nacional y también autonómica la propuesta que hace el gobierno la propuesta que hace el gobierno que por cierto quiero agradecer al señor vicepresidente o vicelehendakari y consejero de seguridad que nos enviara

para que nos compartiera cuáles iban a ser las líneas generales del decreto que están pensando aprobar

no es muy distinta no es muy distinta de lo que ustedes plantean en su propuesta no es muy distinta y además parten de la misma filosofía

una filosofía con la que podemos compartir ciertos elementos pero en la que yo creo que es necesario y así se lo hice saber

en la que también es conveniente que se solicite el asesoramiento no solamente del observatorio del juego para cuestiones de salud pública sino también de las autoridades de defensa de la competencia

el punto tres de la exposición de motivos de su propuesta que insisto es muy parecida a la que defiende en este caso el gobierno y la que el gobierno va a desarrollar en su decreto

regulación tendente a la prohibición de la publicidad todo ese tipo de cuestiones el horario de apertura que es otra cosa con la que se juega mucho no horarios de apertura

son cuestiones en las que las alarmas de cualquier tipo de autoridad razonable y competente de defensa de la competencia eso le hace saltar las alarmas

bien motu propio aprobar un informe o bien en su caso luego recurrir este decreto ante las autoridades judiciales por eso creo que si efectivamente después de realizar un estudio se entiende que hay que establecer distancias mínimas

o una prohibición de la publicidad creo que tampoco deberían ir por ahí las medidas pues hombre entonces es conveniente que se cuente con un asesoramiento

antes o después en los tribunales también de la propia unión europea

ante el consejero de seguridad que busquen el asesoramiento y soliciten un informe de la autoridad vasca de la competencia que para eso la tenemos y su función es

en este tipo de cuestiones la propuesta del gobierno por tanto me parece que es continuista a lo anterior y yo creo que hay ciertas cuestiones que se podrían depurar bastante solamente tenemos o conocemos las líneas generales que son las que ha compartido con nosotros el gobierno

pues a lo mejor podríamos también apuntar alguna propuesta la propuesta del gobierno insisto es que comparte esencialmente salvo una propuesta que meten ustedes que es

con estaciones en euskadi y tal y absolutamente en la televisión pública este tipo de cuestiones bueno pues creo que es difícil sobre todo de llevar de implementar como se dice ahora de llevar a cabo pero bueno en todo caso

yo creo que la limitación del número de negocios no es la solución la limitación del número de sobre todo licencias no es la solución además

la idea es que cuando vayan cerrando porque es que esta crisis les ha afectado mucho a este tipo de negocios que insisto son esencialmente presenciales

no es una cuestión que al gobierno muchas veces la pueda conceder o no de manera

pero esa no es la solución por qué porque si tú vas limitando el número de

lo que estás haciendo es artificialmente inflar el valor de las licencias e uso entonces aquí el gobierno

y reduciendo y no concediendo nuevas licencias lo que hace es aumentar artificialmente el valor de las licencias

desde un punto de vista jurídico económico que esa no es la solución cuál es la solución en mi opinión pues mire

lo han dicho ustedes además yo con eso estoy de acuerdo lo principal es el control de accesos y lo principal que también lo ha dicho usted se lo reconozco le felicito y además es una cuestión que

con el resto de registros de autoprohibidos respetando lógicamente todos los derechos de protección de datos de carácter personal pero hay que

la coordinación entre administraciones aquí es fundamental que se interconecte

y hombre eso no puede ser y luego finalmente

políticas de prevención y de autoconcienciación para mí de poco sirve prohibir directamente muchas veces la prohibición sirve para estimular lo prohibido no sobre todo a ciertas edades yo creo nosotros creemos que lo más importante en este campo por eso yo hablaba de la transparencia y de no llevar el sector del juego

por eso nosotros creemos que lo mejor son políticas de prevención y de concienciación políticas de prevención y concienciación para que todos sepamos además de concienciación de

los jóvenes o de las personas afectadas sobre todo a través ya de un proceso quizás algo más clínico

a la hora también de educar a sus hijos y a través de las escuelas y de la escuela pública y concertada

es que de poco sirve limitar cerrar etcétera presencialmente cuando como usted bien dice

se puede estar realizando apuestas todo el día por eso creemos que lo importante es precisamente eso la concienciación y ya luego desde el punto de vista técnico

que la vía ideal la vía idónea es el decreto mire aquí estamos de acuerdo aquí estoy de acuerdo con el gobierno

en euskera y castellano y quitando los encabezamientos y la firma que es enorme pues es menos de una página menos de una página

vicelehendakari menos de una página yo no lo sé luego presentamos estos informes en sede judicial y pasa lo que pasa no pero yo creo que

y un poquito más desarrollado esencialmente lo que dice está bien como resumen

está bien para que lo podamos entender todos pero hombre un informe jurídico tiene que ser un poquito más amplio y más completo

y que a lo mejor puede acabar estando de acuerdo conmigo mire cuando todo esto cuando el debate tan interesante que han traído aquí

y ya finalmente se apruebe el decreto y bueno ya esto entre en vigor y ya el foco mediático quizás desaparezca un poquito

los decretos son recurribles ante la jurisdicción ordinaria si ustedes meten este tipo de cuestiones y las metemos dentro de una ley dentro de una ley que por ciento no conseguirían nunca aprobar en este parlamento con esta mayoría con el contenido que ustedes proponen

solamente podría declararla inconstitucional tribunal constitucional

a una sentencia por la vía de una cosa que se llama la cuestión prejudicial del tribunal de justicia de la unión europea y siempre y cuando hubiera un elemento europeo

desgraciadamente todavía no ve en cambio si esto se aprueba por decreto puede que usted pierda hoy esta votación aquí evidentemente

usted y nosotros lo podremos analizar y podremos recurrirlo ante la justicia ordinaria no sé si le estoy dando ideas al gobierno al final cambiar de opinión y acabarán regulando la perla porque creo que en otra cuestión lo que pretenden hacer pero el regulándolo por ley porque creo que en otra cuestión es lo que pretenden hacer el regularlo por decreto nos da a su grupo y a nosotros y a todos los ciudadanos porque cualquier ciudadano podría hacerlo incluso una asociación de interés relacionada con este sector podría perfectamente plantear un recurso ante la jurisdicción ante la jurisdicción ordinaria creemos que es la mejor garantía en última instancia sobre todo además en un contexto que es que hay que ser realista nos lo recuerdan muchas más curiosamente lo recuerda mucho más la bancada socialista que la propia del partido nacionalista vasco es que no hay mayoría para que esta ley saliera adelante

que ustedes han propuesto así que en síntesis nosotros lo que proponemos es lo siguiente proponemos

proponemos un mercado del juego donde exista una labor por parte de las autoridades públicas de concienciación y de información sobre todo en la escuela y proponemos seguridad jurídica y para ello para que exista verdadera seguridad jurídica solicitamos expresamente al gobierno que

y que presente una solicitud de informe a la autoridad vasca de la competencia si no lo hacen ahora nosotros lo haremos a posteriori en cuanto quede aprobado el decreto solicitaremos a la autoridad vasca de la competencia y si esta no lo estima conveniente lo solicitaremos también a las cnmc a la comisión nacional de los mercados y la competencia que elabore un informe porque una cosa

el tema de procesal administrativo pero con los decretos pasa otra cosa que por cierto tampoco dice el informe del gobierno y es que tanto la autoridad vasca de la competencia como la cnmc como la comisión nacional de los mercados y la competencia pueden presentar directo también contra este decreto que salga del juego en cambio si se hiciera mediante ley no se podría presentar un recurso ante los tribunales ordinarios en síntesis

bueno el problema es que el debate que estamos teniendo ahora yo ahora voy a porque tengo compartir seguramente el tiempo

o en una ponencia parlamentaria también estamos abiertos a hacerlo

poder hacerlo usted ha hecho muchas referencias y me parece normal y es coherente con su ideología por lo menos con la ideología que desde su coalición

contra la que nosotros evidentemente estamos en desacuerdo nosotros no contraponemos el tema del juego

de empresa el juego es una actividad económica y socioeconómica podríamos decir pero que tiene posibles consecuencias patológicas más que posibles las tiene y los datos del observatorio vasco del juego del departamento de salud

encima de la mesa y evidentemente cualquier regulación y por eso digo que

de empresa pero como usted sabe posiblemente mejor que yo

pública de todos y de todas y especialmente de los colectivos vulnerables y como también decía eba blanco no solo son jóvenes evidentemente pero generalmente

entonces para nosotros y para nosotras lo principal por encima del mercado y por encima de la libertad de hacer negocios está la salud pública el interés general

informes y argumentos de la comisión nacional de la competencia lógico que la comisión nacional de la competencia que es un instrumento

mal entendida que va a estar en contra de cualquier regulación que limite comercial porque generalmente es su actividad decía luego también

entre otras medidas está el real decreto de publicidades de juego aprobado por el gobierno de españa pero le he dado también el dato de bizkaia en el año dos mil dieciocho de veinticinco millónes de euros destinados al juego diecisiete coma cuatro fueron en el canal presencial de ahí está la importancia solo si vemos los datos de bizkaia

del juego para prevenir de sus consecuencias

breve porque no tenemos tiempo para más la aceptaríamos con gusto en este parlamento porque como usted dice

más restrictivas que la nuestra el horario de apertura es fundamental

todos los estudios acerca de este tema demuestran que abrir a primeras horas de la mañana es nocivo para los colectivos

pero es un tema que es muy escaso en lo que está trabajando el gobierno vasco que también evidentemente

que tuvimos pero bueno que nos resulta insuficiente porque para eso está esta cámara para debatir sobre leyes

esta proposición de ley iba a pasar todos los procedimientos

del estado que como usted seguramente sabe ha pasado por el consejo de estado y ha pasado también por la unión

de la competencia de la comisión de competitividad de la unión europea pero los ha pasado por tanto esta ley también esta proposición de ley también los pasaría y por último el tema de la prevención y de la sensibilización es fundamental pero es que para la prevención y la sensibilización deberíamos de ser todas las personas en esta sociedad iguales y no lo somos no llegan igual a las personas y a los colectivos vulnerables las campañas de sensibilización y prevención que a otros colectivos por tanto

hay que regular para evitar las consecuencias nocivas del juego nada más eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea señor gordillo no he logrado entenderle muy bien

este debate merece una reflexión en esta cámara van a votar en contra pero tampoco he encontrado en su intervención argumentos lo suficientemente solventes como para que deriven en ese voto en contra hubiera entendido una abstención pero según su intervención no entiendo su posición la posición de su grupo

es un decreto entre otras cosas porque dice además que los decretos se pueden recurrir si no nos gustaran por mayoría el trabajo que pueda salir de esa ponencia

y que mejor decretos que leyes pero sabe dónde estamos estamos en una cámara legislativa además del control y el impulso al gobierno legislamos legislamos los anteproyectos que nos trae el gobierno

y todo eso se puede salvar como he dicho en la primera intervención con un buen trabajo en la ponencia sirve por una parte para escuchar a los agentes sociales que nos pueden aportar mucho nos pueden aportar mucho conocimiento en torno a esto y además sirve para ponernos de acuerdo o

mediante esos trabajos pero si usted renuncia a todo eso porque hay una mayoría absoluta pues lo siento pero los casi cuatro años que le quedan

decretos desarrollen los decretos que quieran y vayámonos todas a casa

el juego es un problema es un problema dice que no están en una posición ni en otra

bueno el juego es un problema y nosotras siempre hablamos de abusivos de conductas que pueden derivar en una adicción del control de riesgos y daños no estamos diciendo que nadie puede jugar

con responsabilidad y hay que ser muy consciente que esto muchas veces crea un auténtico problema que es una

que crea la adicción lo hemos dicho en el primer turno

pero sí que es cierto que no olvidemos que muchas de esas apuestas deportivas que están en auge ahora entre chavales y chavalas se hacen a través de máquinas en los propios bares o en los propios

y chavalas que puede derivar en nada porque van a pasar la mañana y apuestan pero en muchas otras ocasiones por desgracia deriva en cosas

en una ponencia lo que no entiendo es que vuelva a pedir otro informe mire el observatorio del juego

algunas por este grupo el tiempo que lleva en marcha se han dedicado todo el tiempo a analizar y a presentar informes qué más informes

un acuerdo firmado en esta cámara por mí misma y los dos grupos que hoy en día sustentan al gobierno

ya hace dos años le pedíamos al gobierno que dentro de ese observatorio presentase en el plazo de un año un estudio que recogiese equis cuestiones entre otras cosas el análisis de impacto sobre qué grupos impactaba más menos

le pedíamos que además lo llevase al consejo vasco de adicciones que no nos hemos reunido

medidas correctoras que es lo que llevo diciendo varias veces le pedía campañas en universidades y en centros docentes

de adicciones del año dos mil dieciséis dos años y aquí nada tiene que ver la pandemia porque esto se tenía que haber presentado el catorce de febrero de dos mil veinte

estudios planes órganos organismos y demás tenemos como para poder tomar medidas

si realmente consideramos y creemos que de estas conductas pueden salir problemas como los que están saliendo sobre todo entre los chavales

zurea da hitza muy bien muchas gracias señora presidenta bueno aquí me tienen haciéndole el trabajo al gobierno

propongo además realizar una actividad si quieren dentro de este parlamento al margen para tipo también seminario para algunas cuestiones formales de tipo ya más jurídico que yo creo que es interesante que tengamos

y que le va a impedir a usted pues sacar adelante esta propuesta no vamos a ser nosotros precisamente cierta es una cosa que usted está viviendo ahora además cada vez con más fuerza en la mesa o sea que digo por los acuerdos de mesa que nos llegan o sea que no sé está bien

yo creo que en este parlamento entre otras cosas y puedo estar de acuerdo con esa concepción estamos aquí para discutir y oiga para encontrar la mejor la opción posible

porque entendemos que la propuesta que se hace no es el mejor instrumento jurídico para la regulación de este tipo de cuestiones no creemos que a través de una ley se tenga que

meter en una ley una serie de cuestiones como son los controles

de horarios y demás que igual hay que hacerlas pero este tipo de cuestiones vuelvo a insistirle hay que hacerlas luego de unos informes de las autoridades de competencia que al no le gusta

de ese neoliberalismo

de hecho la principal conclusión a la que llega el informe

la principal conclusión a la que llega precisamente es que sí que efectivamente hay que intervenir en el mercado del juego y una de las propuestas que dice es oiga limitación del control de accesos

por eso las autoridades de defensa de la competencia no buscan solamente

lo que quieren es que haya un mercado en competencia respetando una serie de valores entre ellos evidentemente está la salud pública por supuesto que está la salud pública eso es una autoridad

y por eso digo que es mejor pedir un informe no solamente informes de tipo si quieren sociológico político a lo mejor o incluso efectivamente médicos porque evidentemente aquí

la ludopatía sino que también hay que tener en cuenta que este tipo de cuestiones pueden ser ese tipo de medidas pueden ser luego

por eso nosotros décimos que haya seguridad jurídica porque estas cosas hay que hacerlas bien por tanto nuestro criterio es ese

yo creo por tanto que la vía óptima es oiga la elaboración de un decreto

debería consultar con la autoridad vasca de la competencia que es lo que nosotros proponemos y luego a partir de aquí cuando se apruebe el texto nosotros también lo miraremos y en su caso lo recurriremos evidentemente

la mejor técnica legislativa en este caso como ya hemos dicho creemos que es

la vía del decreto la vía reglamentaria esa es la cuestión que hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta pues evidentemente

pues ahí hay uno muy importante que será el tema del control de accesos que serán también luego las políticas

que para eso estamos nosotros aquí para eso estamos nosotros aquí para a través de las medidas de impulso político solicitar al gobierno que lleve a cabo este tipo de políticas nosotros creemos que una prohibición radical

de muchas legislaciones bien efectivamente hay que dotar de medios para proteger la salud pública pero hombre aquí también está el tema de la libertad está libertad de empresa pero también la libertad de las personas

usar los servicios de una empresa de juego de manera razonable y moderada

ese es el argumento que nosotros seguimos y esa es la razón por la que nosotros votaremos en contra muchas gracias

el grupo socialista ha votado en contra de la proposición de ley compartiendo el criterio del gobierno de considerar mejor procedimiento de revisión y adaptación normativa

a las demandas que desde la ciudadanía se hacen para que los juegos de azar las apuestas deportivas el uso del dinero no derive en conductas contrarias a los valores de la educación de la convivencia de las personas también la suficiencia en la consecución de las necesidades básicas de las personas o en la salud compartimos con el ochenta y ocho por ciento de la población vasca que el juego no es bueno para la sociedad

a los más jóvenes que hay demasiadas oportunidades para jugar

reducir y controlar el acceso al juego y su excesiva publicidad según los datos reflejados por el observatorio vasco del juego los hábitos de juego de la población vasca demandan una importante revisión de la intervención pública en cuanto a su regulación

la rigidez de una ley por la ductilidad de un reglamento el juego puede asociar adicciones causar problemas económicos

angustia y otros trastornos por todo ello y compartiendo que la iniciativa presentada sí tiene valor político

derivar la proposición de ley a la revisión y modificación reglamentaria lo consideramos más adecuado y eficaz para los cambios que se necesitan hoy

que puede cambiar con rapidez es evidente que el gobierno tiene voluntad compartir estas modificaciones y de ser transparente así lo ha hecho recientemente con todos los grupos parlamentarios dándoles a conocer cuáles son también no solo

también su propia posición en relación a lo que considera que es oportuno modificar

de la sociedad y por lo tanto la vía del reglamento no pretende reducir la participación o no pretende evitar la participación o las consideraciones que haya que tener desde

pretende hacerlo como lo he tratado de justificar de una manera más ágil

pero por supuesto tratando de compartir muchas de las cosas

evidente que el debate de hoy sirve tiene utilidad porque ha fijado buena parte de los elementos claves que hay que modificar y en esa línea está trabajando el gobierno y por lo tanto

preferida por algún grupo de esta cámara sí por otras vías la participación y la transparencia está asegurada de todos los grupos de este parlamento eskerrik asko

de la sociedad por la proliferación de establecimientos de juego por la necesidad de protección de los colectivos más vulnerables menores jóvenes personas con capacidades diversas personas posiblemente aquejadas de ludopatías etcétera en definitiva

de salud y de orden público compartimos también la creciente demanda social por seguir regulando seguir ordenando el sector del juego y en ello está gobierno vasco sin embargo

la propuesta presentada por elkarrekin podemos ni en fondo ni en forma y por ello no le hemos dado el pase con nuestro voto a una vía que de antemano entendemos que no es la adecuada porque la vía

la vía de la modificación reglamentaria la vía reglamentaria y la de la planificación porque entendemos que se ajusta mejor al aquí y ahora es decir a la realidad socioeconómica de euskadi

inició hace un año hace más de un año un proceso de modificación reglamentaria y de la planificación que culminará en breve

en este asunto en segundo lugar porque el reglamento como se ha dicho es un instrumento de ordenación más flexible

porque la ley debe regular aspectos estructurales o con vocación de permanencia como hace nuestra ley vasca del año noventa y uno sí pero el reglamento es el que debe reglar los aspectos cambiantes como es el caso

el caso del ministerio de consumo del estado liderado por unidas podemos que recientemente ha aprobado un real decreto que aprueba un reglamento del juego es decir utiliza la vía reglamentaria y no la modificación de la ley

elkarrekin podemos también otras comunidades autónomas están modificando su normativa para introducir la técnica a la planificación es decir una prueba más de la idoneidad de estas vías

que la tiene ajustada a nuestra realidad a la realidad de euskadi no basado en meras suposiciones o percepciones sin importar tampoco fórmulas de otros lugares

entre otros en el plan de acción para el fomento del juego responsable y

del juego problemático es decir una base jurídica y técnica sólida que evite que dé mayor seguridad jurídica

realidad a la que entendemos que no se ajustan del todo las medidas propuestas por elkarrekin podemos porque en parte o como digo no se ajustan o producen efectos colaterales no deseados como por ejemplo el traslado de locales a fuera de los centros de las ciudades que pueden crear concentraciones no deseadas

además con carácter más estricto por ello el gobierno vasco avanza en medidas entre ellos en el control de acceso a los locales para menores personas autoprohibidas avanzando en la obligación de control en todos los locales también en la publicidad del juego en la inspección y control y además ya existe un recargo que propone elkarrekin podemos un recargo

las medidas en las que está trabajando el gobierno vasco son conocidas por los grupos por todo ello entendemos que son mucho más

por forma y fondo que está siguiendo el gobierno vasco un proceso

con otras administraciones con otros gobiernos también con el gobierno del estado un proceso en el que se están defendiendo las competencias autonómicas

recentralizadoras un proceso transparente del que incluso se ha dado cuenta a los grupos parlamentarios aquí en la cámara para su explicación y aportación otra cosa es que no satisfaga su grado de participación pero aquí de lo que se trata es de seguir ordenando el juego de seguir ordenando el juego

y desde luego no nos vamos a perder tenemos claro que no nos vamos a perder en vías que de antemano sabemos que no son las adecuadas porque aquí no se trata ni de egos ni de protagonismos ni de tener se trata de dar la mejor solución posible

gracias presidenta buenos días señoras señores parlamentarios a nadie se le escapa que es difícil prever qué vacunas van a llegar al país vasco cuándo

todos intuimos que el proceso de producción y distribución es sumamente complejo y que la demanda es enorme y que al menos de momento también la oferta es limitada

pero esta notable incertidumbre no puede servir de excusa al gobierno vasco y a la consejería de salud para justificar una palmaria falta de protocolo a seguir total hasta la tarde de ayer y algo menor gracias a la presión de los grupos de la oposición que hemos sometido a la señora sagardui casualidad

el manejo de los tiempos es una seña de identidad de este gobierno pero aun quedan muchas cuestiones sin respuesta muchos asuntos que resolver

mayores de cien años noventa ochenta setenta siguen otras franjas de edad se habla de trabajadores esenciales pero no sabemos quién es quién

esta misma semana hemos leído en un medio de comunicación declaraciones más que preocupantes de personas que conocen bien lo que realmente está ocurriendo por ejemplo en centros hospitalarios o en los cuarteles de ertzaintza

pero es cierto que lo que se ha comentado es que no vacunarán a los mayores de cincuenta y cinco años tampoco a los que han pasado

entonces nos cabe la duda de que acaso habrán pasado un test serológico porque ustedes dicen que es que ya tienen anticuerpos creemos que este baremo selectivo que ustedes han adecuado a la ertzaintza

a no ser que claro como lo tienen que hacer en su día libre no hayan llegado todavía a cubrir toda la franja que quieren por otro lado también desde el sindicato de enfermería desde satse denuncian una falta de estrategia

si es preciso con nombre y apellidos desde el sindicato médico se utilizan palabras aún más gruesas el proceso está siendo desastroso y caótico

queremos y hay otras voces que apuntan que se está actuando a golpe de queja una osi por ejemplo recuerda que el porcentaje de profesionales vacunados es menor que en la osi vecina

alguien denuncia que también han de inocular a profesionales de la sanidad privada

además es evidente que la diferencia entre los porcentajes de vacunación de una osi a otra y de un hospital a otro es más que notable

el hecho probado de que en algún centro hospitalario estén todos los profesionales vacunados mientras que por ejemplo en la red de salud mental no alcance ni el cinco por ciento

carencia de hoja de ruta ausencia de criterios y objetivos definidos confusión y mucho malestar y lo tenemos porque ustedes no tienen protocolo

ante un asunto de tanta relevancia como este que hoy discutimos aquí como decía la excusa del gobierno no puede ser que desconozca qué cuándo y cuántas vacunas van a llegar a euskadi porque es obligación de la consejería tener previsto qué hacer

sin duda ese debería de ser uno de los trabajos prioritarios en el departamento de salud

que como denuncian sindicatos y organizaciones profesionales del ámbito sanitario

sobrantes cómo es posible que sobren dosis señora sagardui a qué estamos jugando

al no publicar un protocolo preciso y muy detallado de vacunación en todo el territorio nacional aquí deberíamos de saber ya el orden de vacunación de nuestros familiares en situación de especial vulnerabilidad

de los policías que nos atienden en carretera o del panadero que cada día nos atiende detrás de un mostrador no voy a juzgar las decisiones que se han tomado hasta la fecha

seguir con los profesionales sanitarios que trabajan en primera línea aunque durante tanto tiempo hayan permanecido en el olvido por ejemplo esos ancianos que no viven en residencias aunque casi nadie sepa quién es el personal de primera línea

o la persona responsable de la biblioteca de cualquier hospital también la mujer de la limpieza el cuidador que atiende a una persona mayor la cajera del supermercado

a estas alturas de la pandemia ustedes deberían tener claro cuáles son los profesionales esenciales y cuáles no y deberían dejárnoslo claro también a todos nosotros deberíamos saber qué va a suceder con los profesionales de la sanidad privada

también trabajan en primera línea con enfermos crónicos con miembros de las fuerzas de seguridad del estado con bomberos con periodistas y peluqueras

con los profesores de bachillerato y también con nuestros hijos algunos de ellos en esa franja de edad en la que parece campar más a sus anchas las nuevas cepas del virus

que en el más corto espacio de tiempo posible dé cuenta en esta misma cámara y con todo lujo de detalles del orden de vacunación previsto también de los objetivos que se han fijado del horizonte temporal con el que trabajamos

queremos que elaboren lo antes posible es terrible decir esto casi dos meses después de iniciada la campaña de vacunación pero queremos que elaboren lo antes posible

a seguir como les digo con todo lujo de detalles ese documento en el que ha de quedar meridianamente claro qué se hace con las dosis sobrantes aunque debería ser la garantía de que en el futuro

y como aspecto fundamental que ha de acompañar al protocolo es imprescindible que diseñen en marcha ya una potente campaña de comunicación e información cada día escuchamos noticias casi de todo tipo acerca de esta vacuna y de la otra si de esta me fio y de la otra algo menos que la rusa ni tocar

y otra para otros eso sí nos da todo lujo de detalles del porcentaje de efectividad

no han considerado desarrollar una campaña de información para que la confusión no campe a sus anchas entre la ciudadanía

en lugar de como un rebaño dócil al que no hay que dar explicaciones absolutamente de nada señoras y señores de los partidos que conforman el gobierno hagan un verdadero ejercicio de responsabilidad y apoyen

los problemas ligados a la campaña de vacunación que cada día inundan los medios de comunicación están generando

entre quienes ven en la vacuna el punto de regreso a la normalidad que tanto ansiamos un protocolo detallado y preciso máxima transparencia colaboración con quienes tengan algo que decir con quienes sepan de estas cuestiones e información a la ciudadanía creemos que no es mucho pedir eso es lo que esperamos de este gobierno y de su consejería de salud

sin más seguiré atentamente sus excusas si es que tienen a bien ofrecérnoslas

y detallado y la opacidad con la que se está actuando para calificar de normales los muchos problemas y polémicas que están jalonando la campaña de vacunación
iniciada a finales de año muchas gracias eskerrik asko martínez andrea garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak legebiltzarkideok bueno interpelé hace dos semanas a la consejera

la pregunta concreta de si iba a asumir en primera persona responsabilidades por las irregularidades que se habían detectado hasta ese momento conocidas en el hospital de santa marina y basurto que acarreó la dimisión

directores gerentes y también si se iban a depurar

de salud al objeto también de recuperar la credibilidad y la confianza en una institución muy valorada

que represento que estas irregularidades deben aclararse las ya conocidas y las que se puedan producir en un futuro y que en este sentido es necesario llegar

y depurar todas las responsabilidades que correspondan

duguna en relación a las vacunaciones irregulares como he señalado creemos que es necesario llegar al fondo de este asunto creo que todavía

no me voy a referir de manera amplia a este asunto puesto que ha sido tratado en este parlamento y mañana formulo una pregunta también a la consejera pero si voy a hacer una pequeña referencia en relación a las irregularidades en basurto y en santa marina creo que hay

al número de días en que se produjeron las vacunaciones en basurto a la vacunación de la doctora collazos si se circunscribe al día quince como ha manifestado la consejera y el propio lehendakari que respalda que se

el día quince por qué lo hizo ese día cuando no está justificada su vacunación porque no es personal de primera línea

no es personal de primera línea en relación a las vacunas de santa marina yo creo que también tiene que quedar claro que una vez autorizada la vacunación de todo el personal

cómo se produce también toda la autorización y el envío de las dosis exactas para vacunar como digo a la totalidad de la plantilla en este sentido en la moción que traemos hoy a debate en esta cámara presentamos en los dos primeros párrafos las ideas fundamentales torno a aclarar todo lo que tiene que ver con las irregularidades en las vacunaciones conocidas hasta la fecha como las futuras que se puedan conocer esperemos que no pero que si hay irregularidades obviamente se aclaren en ese sentido pedimos una transparencia absoluta en los expedientes

se están llevando a cabo y sobre todo que se llegue el fondo del asunto conociendo claramente las causas

el contenido los actores de estas irregularidades el conocimiento hasta dónde llegó por parte del departamento de salud con la consejera a la cabeza

como ya hemos reclamado sistemáticamente que se depuren las responsabilidades que correspondan creo que también es

reiterar la exigencia de un compromiso ético a todos los altos cargos del gobierno

al personal directivo para que se cumplan escrupulosamente los criterios protocolos de vacunación

las responsabilidades en primera persona de aquellas acciones que hayan podido permitir o facilitar las irregularidades que se hayan podido producir en cuanto al proceso de vacunación como también hemos destacado en reiteradas ocasiones desde este grupo consideramos que

y es una situación que ya está siendo percibida por buena parte de la ciudadanía por

el otro día conocimos las críticas concretas que se hacían por parte de los sindicatos de las asociaciones profesionales organizaciones profesionales sanitarias hay mucho desconcierto sobre todo en colectivos

y también en personas que están en situación de riesgo por lo tanto podemos decir que se ha instalado claramente la desconfianza en la ciudadanía

las cosas claras hay que recordar que esta campaña es una campaña absolutamente singular es una campaña singular primero porque estamos

ordinaria en la que hay muchas cosas que todavía se desconocen todo está sumido en una incertidumbre las dosis son insuficientes

hay que inocular una segunda dosis para que la vacunación sea efectiva es lo que se llama revacunación por lo tanto no es una campaña ordinaria y por eso les recordamos continuamente a la señora consejera y al gobierno vasco que por no ser una campaña ordinaria sino singular

extraordinaria pues los criterios más que nunca tienen que estar claros y ser

siendo aparte del conocido ritmo lento de esta vacunación que nos lleva a que seamos la tercera comunidad menos vacunada hay que señalar que todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación en euskadi bueno que se supone que tenía que haber diseñado

pero no está diseñado porque vemos que los criterios cambian decía que todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación en euskadi está envuelto en una absoluta

la falta de transparencia es absoluta la descoordinación es evidente no hay una planificación los criterios no están claros

grupo a otro sin haber finalizado la vacunación del grupo anterior no hay criterios claros como están denunciando los profesionales en relación a las dosis sobrantes no puede ser que en un escenario de escasez de dosis cuando

establecer un protocolo específico para saber qué hacemos con esas dosis sobrantes en los hospitales cuando sobran y que no se tenga que andar en el último momento al tuntún

la dosis o esas dosis eso está pasando señora consejera y creo que esto es de una gravedad que hay que reconocerlo y hay que poner medidas para que esto no sea así llamar a unas personas de reserva yo no sé cuál es la solución porque les compete a ustedes buscarla pero lo que no puede ser es que en el último momento se esté buscando a personas para ver a quién se les

con profesionales que me lo están trasladando continuamente que este es uno de los problemas que actualmente en los protocolos que no están claros qué hay que hacer con las dosis sobrantes porque no está el listado de personas

sobrantes vemos que no ha existido un cronograma el desorden la descoordinación

consejera en relación a los alojamientos de carácter residencial para personas con discapacidad se lo pregunté el miércoles pasado se lo pregunté ayer y usted no me dijo absolutamente nada en relación a esta cuestión

están vacunados pertenecen a la osi de galdakao pero los que están en álava

distintos por qué en algunas organizaciones sanitarias se ha vacunado al personal de primera línea y en otras o está el ochenta por ciento de la plantilla total vacunada no solo profesionales de la primera línea y en otros todavía se está con las profesiones

nos preocupa señora consejera como usted ayer nos dijo que todavía la vacunación de los profesionales de primera línea

afirmó que la vacunación de los profesionales de primera línea

está claro es que los resultados no son los esperados ustedes no están a la altura de las circunstancias

y ayer nos dijo que ayer mismo a profesionales de la sanidad privada

ocurrirá establecer un criterio discriminatorio con el resto de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque tampoco nos ha dicho nada de la policía nacional de la guardia civil y del ejército me imagino que también serán considerados colectivos esenciales y que sus ensoñaciones y ansias

a establecer le digo por avisar y porque quede esta cuestión clara ningún tipo de discriminación con este colectivo porque ya le digo estaremos atentos que igual que la ertzaintza que es obvio que se vacunen y el resto de policías locales

guardia civil y miembros del ejército que prestan su servicio y muy importantes en el país

a nivel general y que se han establecido criterios por edad señora consejera sí que creemos oportuno que ya de una vez por todas

al proceso de vacunación en euskadi se tomen las medidas pertinentes para ello

que se van a vacunar y dentro de los grupos que se establezcan claramente los colectivos

incluyen y finalmente señora presidenta voy a acabar sí nos parece importante que de cara a mejorar la accesibilidad a las zonas rurales

foral de navarra que es una unidad móvil para poder acercar la vacunación como digo a las zonas rurales es un dispositivo que está funcionando bien que es la primera comunidad en donde ha puesto en marcha y creo que sería una iniciativa muy interesante para y mejorar la accesibilidad de la vacunación en zonas en donde también hay una población mayor que tiene dificultades para acercarse a los centros de salud

póngase las pilas que creo que ya es hora y que nos estamos jugando mucho todos y que este

egun on legebiltzarkideok nuestro grupo parlamentario ha hecho

a la moción del partido popular ciudadanos que acaba de explicar

la señora garrido porque es verdad que durante las últimas semanas hemos asistido

irregulares que ha generado un gran malestar con razón entre la sociedad y especialmente entre los profesionales tanto sanitarios como sociosanitarios y también

muy agotados a todos por nuestra parte hemos pedido explicaciones para que se aclarase todo lo sucedido y para que se asumiesen todas las responsabilidades que se tengan que asumir

sobre todo para que la sociedad no se quede con la sensación de que aquí no pasa nada cuando se vacuna a quien aún no se tiene que vacunar mientras miles de personas que están en primera línea

y creemos que la sensación que va quedando es precisamente esa

o casi nada al gobierno le han salido dos caraduras entre las filas de sus altos cargos y listo como los pusimos y a otra cosa el resto por lo que hemos podido escuchar en más de una ocasión

ganas de revolver o de tocar las narices la consejera se quejaba en la comisión de salud la semana pasada de que ya había dado

en una comisión y en un pleno de control a las preguntas de los grupos parlamentarios que era la tercera vez que daba explicaciones y es cierto eso sí

sin responder a preguntas concretas que le hacíamos algunos grupos cuando planteamos que la consejera conocía que se estaba vacunando a todo el hospital

dudas razonables nos dicen que no lo conocían cuando planteamos bueno nosotros creemos que sí lo conocían

la directora de osakidetza y la propia consejera donde se dice que se va a vacunar a todo el personal

a todo el personal que corresponda según el protocolo no a todo el personal cuando les décimos que esa versión a nosotros no nos parece creíble que los mensajes nos parecen claros que los números de vacunados que se le van dando desde el hospital llaman la atención o deberían haber llamado la atención

no nos parece creíble que no les llamase ni siquiera la atención la expresión vamos a vacunar a todo el hospital nos dicen que no es una cuestión de versiones

y punto mientras tanto el presidente del partido nacionalista vasco

y al que pertenecen los dos altos cargos dimitidos nos decía ya previamente por la radio que el tema estaba zanjado que nos dedicáramos a otra cosa que ya estábamos molestando demasiado

a lo sucedido hace algunos años ante el trabajo de la oposición entre ella mi grupo parlamentario para que se conociese lo que estaba pasando con las ope fraudulentas

más que una estrategia de acoso y derribo porque la oposición estaba nerviosa ahora se nos dice que el tema está zanjado y lo único que hacemos es poner en marcha una caza de brujas

que molesta que se inventa que acosa y derriba que busca una caza de brujas nada más lejos de la realidad y así se lo he explicado también a la consejera cuando he tenido

pero nosotros no vamos a comulgar con ruedas de molino la responsabilidad de lo sucedido con las vacunas irregulares no recae solamente en los dos exgerentes de basurto

por las que han tenido que dimitir no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera habido una pésima gestión por parte del departamento de salud y eso exige responsabilidades

no son dos ciudadanos que se han saltado la norma les han pillado y ya está eran dos gerentes que forman parte

dependiente del departamento de salud y del gobierno vasco la decisión de realizar esas vacunaciones irregulares no la podrían haber ejecutado

hubiesen hecho bien su trabajo alguien decidió vacunar indebidamente en basurto

en la historia clínica algo que es absolutamente obligatorio alguien envío a santa marina vacunas suficientes para vacunar a todo el mundo personal y pacientes

el dimitido director de ese hospital no se sacó las más de quinientos vacunas de la manga de la chaqueta hay por lo tanto responsabilidades más allá de su gestión

de ese hospital se ha visto en nuestra opinión que no hay un buen control sobre las vacunas sobre su distribución

sobre la planificación de viales y dosis sobrantes y todo ese desaguisado no es

una alta responsabilidad en cuanto a las decisiones que tomaron en sus respectivos hospitales censurables y está bien que dimitan o en el caso de no dimitir sean cesados por el gobierno como en el caso del señor maiz está bien

y en paralelo hay una responsabilidad del departamento y del gobierno a la hora de no haber evitado estas y otras situaciones que hemos conocido eso es lo que pedimos

y que se conozcan las respuestas a todas las preguntas planteadas porque no se han respondido pero más allá de las responsabilidades todo este asunto ha dejado al descubierto una mala gestión y planificación que se está haciendo con la campaña de vacunación frente al covid y eso hace necesario

en la misma pensamos que no hay una buena planificación no hay una buena coordinación hemos visto en estos dos casos cómo salud pública se encarga de gestionar las vacunas

sus necesidades pero pensamos que alguien tendrá que planificar cuántas se mandan a cada osi para qué colectivos para cuánta gente cuántas a cada centro todo teniendo

en cada momento concreto pensamos que esto no se está haciendo bien y ha tenido consecuencias una de ellas lo que ha pasado en estos dos hospitales hace dos semanas empezamos a escuchar las quejas de diferentes profesionales de osakidetza

sobre la falta de vacunas en esos ámbitos al personal de primera línea cuando estaban viendo que en otros centros sí se vacunaba

y no ha sido así y entendemos las dificultades pero pensamos que cuando se anuncian las vacunaciones se hace propaganda cuando no se cumple no se dice nada

y repito que entendemos las complicaciones para cumplir determinados plazos hace falta que el gobierno sea claro y tenga una planificación

para que esto no se convierta en una suerte de los juegos del hambre una competición por ver cuándo nos vacunan a cada colectivo hoy se movilizan los trabajadores por ejemplo de las ambulancias trabajadores que están absolutamente y que en su mayor parte no han recibido la vacuna y esto no es comprensible nosotros proponemos por lo tanto también en nuestra enmienda que la planificación de la vacunación

sea más clara dinámica por supuesto porque entendemos que tiene que ser dinámica y comprendemos las dificultades que tiene

pero se puede hacer mejor y se debe hacer mejor porque está generando un gran malestar sobre todo entre los profesionales

creemos que se debe mejorar muchísimo en esta cuestión pensamos que lo que ha pasado en los dos hospitales

cuestiones a dilucidar y responsabilidades a asumir es consecuencia de que se empezó muy mal

de la vacunación de un virus que no es una vacunación

y que necesitaba una planificación mucho más especializada una planificación sobre la que el departamento debería haber estado encima y que hemos visto que no ha estado eso es lo que proponemos en nuestra enmienda

muchas gracias presidenta hace menos de un año

desde entonces en esta cámara mi grupo siempre ha dicho lo mismo

plena en quienes están tomando decisiones para salvar nuestras vidas sean del partido que sean sea del gobierno que sea no es afinidad a siglas

que cualquier partido debe tener es el virus

cuando el primer estado de alarma tenía como órgano decisorio el gobierno de españa en junio en julio aunque fuera campaña lo dijimos en agosto y en septiembre cuando se preparaba un nuevo gobierno y lo repetimos desde entonces cuando los socialistas

que tiene como primer reto garantizar la salud y si hablamos de responsabilidad política esta es la primera que debiéramos tener los setenta y cinco parlamentarios de esta cámara

del grupo socialista generar confianza y la segunda que es la primera del gobierno garantizar que todos sus cargos públicos y de confianza sepan que son servidores públicos sin ningún privilegio los socialistas lo décimos con rotundidad cero comprensión contextualización

con quienes no saben estar a la altura de la responsabilidad más grande que hayan tenido que gestionar cero nadie les ha pedido remedios mágicos porque no existen pero sí les exigimos y nos exigimos máxima ejemplaridad en este momento inédito y crítico de nuestra historia así que consejera lo primero

pero hoy no es siempre hoy es ahora y como se está haciendo sin contemplaciones

siempre explicar que nos tenemos que vacunar cuando nos toque y que no perdamos ni un segundo en explicar lo inexplicable y sí con una estrategia y sí cambiándola una tres o veinte veces las que sean necesarias porque la pandemia y las reservas se lo exigen no somos ajenos

ha provocado en determinados colectivos especialmente entre el personal sanitario y de forma singular entre algunas organizaciones que lo representan no somos insensibles a esa preocupación que también es la nuestra y que nos consta también está presente en el trabajo diario de los representantes y responsables del departamento y de osakidetza concluiremos todos que esta no es una tarea sencilla

sobrevenidas e imprevisibles aceptar esto no debe ser una excusa para que no existan que existen

protocolos que traten de abarcar el mayor número de situaciones y evitar cualquier desajuste otra cosa es que se pretenda utilizar este momento políticamente para pretender

llevamos meses hablando del proceso de vacunación y sus protocolos y varias semanas también hablando en torno a las irregularidades que el propio departamento detectó

de vacunación así como las medidas que adoptó sin embargo a pesar de toda la información recibida

en el terreno de la especulación de la conjetura donde vale prácticamente cualquier afirmación

de algunos de los grupos de la oposición en primer lugar en relación a la propia estrategia

en esta cámara hay quienes han llegado a decir que creen que ni hay estrategia ni protocolos se ha dicho está en el diario de sesiones o que si los hay tienen dos páginas pero este debate no puede ir de lo que alguien quiera creer o no creer este debate de lo que tiene que ir es de hechos y en base a esos hechos esas afirmaciones son simplemente ajenas a la realidad existen los documentos

el primero la estrategia de vacunación frente a la covid diecinueve en españa y sus sucesivas actualizaciones el segundo

más breve igual que en el resto de protocolos de comunidades autónomas por qué

por lo tanto tal y como hemos dicho siempre tal y como hemos afirmado siempre la estrategia y los protocolos

están ahí y no claro que no tienen dos páginas pero seguimos plantean ustedes en sus iniciativas que se precise con claridad el orden de prioridad de vacunación para grupos pues bien si lo que piden es que exista una priorización de los grupos poblacionales colectivos profesionales sectores y etapas de vacunación eso ya se está haciendo en estos documentos pero siempre hasta donde hoy es posible eso sí si lo que están pidiendo es que esa priorización

simplemente no es posible y lo saben pero les vuelvo a decir

yo simplemente les estoy pidiendo que se lean esa estrategia y que se lean esos protocolos

es la base de referencia de todos los protocolos de todas las comunidades autónomas también de euskadi y en esta estrategia se definen las etapas de disponibilidad de las vacunas se analizan todos los grupos de población y se establece la priorización de los mismos pero este documento al igual que los protocolos autonómicos es un documento vivo

la última ayer mismo y les aseguro que quedarán unas cuantas más

esta se verá alterada por razones tan lógicas como la medida en que se van autorizando más vacunas en función del número de dosis de esas vacunas que efectivamente acaben llegando

así como por las nuevas evidencias que se determinen por la agencia europea del medicamento y como hemos visto precisamente por eso en esas actualizaciones se van

como se hizo la semana pasada al incluir por ejemplo a los profesionales de centros de día o de ayuda a domicilio o ayer mismo cuando se ha acordado que los siguientes grupos a vacunar

tampoco se establecen referencias temporales cerradas porque obviamente dependerán de todos esos factores es verdad que leyendo sus iniciativas igual ustedes lo que nos quieren trasladar hoy aquí es que no están de acuerdo con esas priorizaciones o criterios y que hay que optar por otros

cuáles pero sinceramente me llamaría la atención

ha sido elaborada por el grupo de trabajo en el que además del gobierno de españa y comités de expertos también están representadas euskadi y otras siete autónomas de las que cuatro son gobernadas por el partido popular y dato curioso a excepción de galicia en las otras tres andalucía madrid y murcia esos gobiernos tienen el apoyo de vox pues bien

poner a la mesa porque ustedes no lo ven claro euskadi cuenta con su protocolo como cuenta con él el resto de comunidades autónomas pero esos protocolos están alineados con la estrategia de vacunación frente a la covid diecinueve en españa y todos ellos están sujetos a sufrir cambios también los de las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan

u órdenes de prioridad cerrados e inmutables para los grupos y colectivos tampoco los de ninguna otra comunidad autónoma porque también les afecta

las dosis que efectivamente acaban llegando y la evidencia científica yo creo que es simple de entender otra cosa es que nos quieran decir que en euskadi no vale lo que sí vale para el resto del mundo léanse por ejemplo las catorce páginas del documento informativo de vacunación

verán que también dice exactamente esto por todo esto nuestro grupo los socialistas vascos hemos presentado junto al grupo nacionalistas vascos

que sobre la realidad de la existencia de la estrategia y protocolos de vacunación insta al gobierno vasco a continuar informando en la comisión de salud del parlamento de las actualizaciones que requieran ser hechas en función de los tipos de vacunas y dosis disponibles así como a garantizar las vacunaciones con las mismas garantías

como rurales y sobre la necesidad de cumplir estos protocolos de vacunación ninguna duda

ya que en caso de que se detecte cualquier irregularidad continúe procediendo a la clarificación transparente de aquellos hechos y la depuración de las responsabilidades que de ellos se deriven
nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi quisiera empezar con un recuerdo a

que fue parlamentaria pero sobre todo fue compañera mía en la diputación de álava y consejera cuando yo fui funcionario en el gobierno vasco pero especialmente a xabi agirre que fue mi presidente de diputación mi presidente de partido mi compañero de escaño y sobre todo mi amigo

vuelvo a la realidad de los que quedamos aquí para debatir y señora garrido el pleno de control es mañana repase lo que ha dicho y verá que parecía que estaba en un pleno de control mire esta moción que pretende inicialmente abordar varias materias aunque parece tener un forzado enlace entre ellas cada una de las mismas podría haber sido

continuar embarrando el campo o intentar mantener un esfuerzo por desestabilizar al gobierno y particularmente al departamento de salud

que es lo que realmente puede interesar a la ciudadanía que no es otra cosa que el plan de vacunación en este sentido nuestra enmienda

que mantenga informado a este parlamento a través de sus comparecencias semanales ante la comisión correspondiente claro y estoy seguro de que usted dirá que eso de que vaya informando semanalmente no le convence

cómo se va a proceder a la vacunación de todos los colectivos qué día y qué hora le va a tocar a usted expresamente qué más quisiera la consejera de salud y todos los trabajadores de osakidetza que eso pudiera ser así ustedes saben como yo

que cada domingo sabemos cuántas van a llegar el lunes y que cuando llegan además vienen conjuntamente con unas especificaciones técnicas que no se habían preavisado

que escaseaba en el mercado porque todo el mundo y en esta era todo el mundo de verdad

según llegó se informó que mejor no moverla mucho porque se podía deteriorar y si el departamento tenía previsto repartirla por residencias que eran el primer objetivo al no poder movilizarla mucho deciden modificar su plan y concentrar la primera llegada de la vacuna en cruces

ya que la concentración de vacunables en un espacio

aunque la consejera nos explicó este tema en una comisión en la comisión siguiente usted le pidió explicaciones de por qué se habían saltado el protocolo inicial

a vacunar a sanitarios antes de lo previsto así nos va si no escuchamos pues bien continúe el culebrón cuando va a empezar a llegar la vacuna astrazeneca

se provoca un debate a nivel europeo cada uno va tomando la decisión que cree mejor y el estado español

cuando ya las primeras dosis ya están aquí a partir de esa decisión hay que replantear la estrategia de vacunación previamente diseñada

que puedan entrar en esos márgenes de edad justo en el momento en que la consejera nos lo estaba contando y esto es verdad

se puede usar para mayores de ochenta años como comprenderán no hay manera de hacer así una planificación más allá de una semana

los ciudadanos y las ciudadanas lo entenderán aunque usted señora garrido se ofenda que lo que puede hacer el departamento de salud es ir informándonos en la medida que ellos tengan información más o menos fidedigna

pero hay que actualizarlo porque las condiciones para la vacunación además son complejas porque añadir a la complejidad de las propias especificidades técnicas de las empresas proveedoras el desconocimiento que cada

lo hace doblemente complejo pero al tiempo hay que sumarle la heterogeneidad compleja por lo menos de los primeros colectivos a los que se está dirigiendo la vacuna

salvo los que plantea cada día la oposición y últimamente especialmente usted señora garrido los colectivos de residencias y personal sanitario están plagados de casuísticas muchas veces no previsibles hay gente de baja personal de vacaciones personas que han pasado o están pasando el covid y muchos más casos si a ello le añadimos que las dosis

que se produjeran que se produzcan pequeñas disfunciones por ejemplo si cuando le toca a un señor de cincuenta y ocho años vacunarse no está porque ese día ha tenido un esguince

pues se queda en casa y se pasará al siguiente que puede estar en su mismo escalón de riesgo o en el siguiente y que además es más joven pero además estaba ya y le iba a tocar un día o dos este hecho es normal y pasaría desapercibido porque además

cuando se reincorpore lo vacunarán pero esa información señora garrido en sus manos

en un elemento al que le mete vatios y hercios una escenificación adecuada

que seguro se produce todos los días eso sí cuando directivos se trata se informa y se

no hace falta pedirle al gobierno transparencia en sus investigaciones sobre vacunas irregulares ni que pida la dimisión o cese de altos cargos que incumplan conscientemente los criterios

a los hechos me remito por eso no le solicitamos que lo haga

y mientras tanto lo que primero empezó elkarrekin podemos pidiendo una comisión de investigación que nadie apoyaba porque el protagonismo

no había otra razón lo continúo bildu proclamando a voz en cuello que se había mentido a la ciudadanía sin saberse en qué y a qué ciudadanía se había mentido pero claro usted señora garrido no podía quedarse atrás necesitaba su protagonismo

fue a alguna clase de arte dramático yo creo que además del método stanislavski y apareció por aquí rugiéndose

simplemente para mantener el campo embarrado e intentar no dejarle trabajar al gobierno con la calma necesaria ante el reto que tiene encima pero su gozo en un pozo

a recuperar su protagonismo solicitando la reprobación de la señora consejera

es grave que llevamos doce meses adelante y atrás

que los contagios van en forma de ondas que se acumulan muertos por esa patología pues bien si es consciente de esa situación también creo que lo lógico es hacer algún esfuerzo

hace lo que cree óptimo por el conocimiento que tiene de la situación y que en cada momento le permite la escasez de vacunas o en su caso algún juez y en esta situación

se genera una tensión social ante lo que nos vaya a ocurrir mañana produciendo

sino un agotamiento mientras usted se dedica en su estrategia política de confrontar con el gobierno

cada día más a teatralizar una indignación ante el gobierno y a sembrar dudas

con objetivos puramente políticos y sin importarle que lo poco de lo que usted diga que pueda llegar a la ciudadanía genere probablemente

más desconfianza en quienes están bregando con la reconstrucción de la normalidad

allá usted pero nuestro grupo seguirá trabajando para generar confianza entre la ciudadanía para que puedan entre tanta niebla confiar en quienes con sus humanos errores están trabajando sin descanso para devolver este país a la normalidad

pero también le debo pedir comprensión ante la tarea que tiene el gobierno que es

pueda darse alguna disfunción y que se ponga de su lado le voy previniendo

mejor tome la de cooperar críticamente con el gobierno el que toma esa posición cuando esto pase todo esto que más temprano que tarde pasará verá que su posición gana ventaja social ahora bien

usted podrá seguir con su estrategia política de continuar tensionando al gobierno

pero en general le recuerdo las estrategias

mientras tanto nuestro grupo seguirá apoyando al gobierno y a la consejera de salud que cuando detecta actuaciones incorrectas en su departamento nos lo cuenta y actúa con decisión

permanentemente de solucionar problemas que ya nos gustaría la imitase la oposición por mucho que lo lleven intentando

la ciudadanía sigue valorando siete coma seis sobre diez la actuación de osakidetza

horrelakorik ikusi eta saiatu gara saiatu gara sé que ahora está de moda ofrecer

yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo que hay que ofrecer certezas creo que nadie puede ofrecer certezas nadie y menos en un mundo cada vez más cambiante y con más incertidumbre lo que podemos ofrecer es honradez

planificación recursos colaboración humildad eso sí podemos ofrecer y sobre todo intentar construir

y colaborar para mejorar nuestras vidas eso sí podemos hacer baina zuek ere hori ez duzue nahi izan pandemia hasieratik eta gero

bueno muchas cosas que decir de todo lo que hemos ido viendo

con un asunto tan importante como es la campaña de vacunación en la que tantas personas han volcado sus esperanzas de recuperar la normalidad hablaba el señor rico de que apoyan lo que ha dicho el gobierno claro que sí señor rico la posición de pnv y pse es comprensible claro que sí

ambos partidos pondrían a funcionar su potente maquinaria para exigir ya mejor ayer que hoy un protocolo de vacunación detallado con colectivos concretos con un orden preciso de vacunación pero por supuesto son gobierno forman parte de él y su trabajo es el de ocultar las carencias de este gobierno y esta es una evidencia que todo el mundo es consciente mejor una cortina de humo que reconocer en público una carencia por cierto tan preocupados por su autogobierno pergeñando ya su particular ley antipandemia como si esto fuera una batalla que se disputa por barrios

de detallar al máximo su particular protocolo de vacunación ese del que dependemos en el país vasco y ese que tal vez evitaría

por un lado hablan de que hay un protocolo ayer en la comisión de salud la señora sagardui dijo que se iba a vacunar a la ertzaintza creo no equivocarme pero en ningún momento

hoy nos hemos enterado de que han dicho que los mayores de cincuenta y cinco años no se van a vacunar y que los que han pasado ya el covid tampoco porque se demostrará que tienen anticuerpos algo que tampoco quedó constado ayer señor rico no gobernamos en andalucía no gobernamos

apoyamos el gobierno del pp sin sillones a cambio pero ahora tomamos nuestras decisiones en ambas comunidades vale por otro lado también cómo no la coalición pp ciudadanos entra en el juego en esta ocasión obsesionada por marcar perfil

habituales en este caso enmendar a la totalidad nuestra moción

exactamente lo mismo que vox pide que no es otra cosa que un protocolo de vacunación desarrollado al máximo preciso concreto nítido ordenado no sería más sencillo votar a favor de nuestra propuesta o haber hecho una enmienda transaccional fíjese nosotros vamos a votar sí a la suya también

que vox se suma a su propuesta del pp en fin al margen de este patético rifirrafe entre unos entran a debatir una cosa otros otra contigo no hablo porque no te ajunto o sea algo que realmente me sorprende en un parlamento en el que todos representamos

partes de la sociedad lo verdaderamente significativo de esta sesión plenaria es que este parlamento

a desarrollar ese protocolo de vacunación y que con la necesaria complicidad de los grupos que lo sustentan el ejecutivo seguirá improvisando jugando con los tiempos retrasando las decisiones más difíciles y vendiendo humo a una ciudadanía a la que cualquiera de ustedes deberían de tratar con más a la que debemos transparencia y compromiso esa transparencia y compromiso que sobra en la calle y tanto se echa en falta en esta cámara esto es lo que hoy

lo que vienen haciendo con el resultado que están obteniendo hoy van a votar más opacidad más imprevisión más improvisación más incapacidad más de lo mismo para lograr lo mismo cero autocrítica que los profesionales de osakidetza están la culpa es de la irresponsable ciudadanía que la curva de contagios crece a toda velocidad o decrece a un ritmo exasperadamente lento la culpa es de los bares y restaurantes de sus propietarios y de sus clientes que siguen llegando pacientes a las uci que siguen muriendo personas víctimas de la covid hemeretzi la culpa es de los jóvenes y no tan jóvenes

la culpa está ahí fuera y miles de personas con el miedo a la enfermedad decenas muriendo cada semana miles de empresarios abocados a la ruina miles de trabajadores en paro o amenazados por el desempleo profesionales sanitarios y no sanitarios saturados una sociedad desesperada con la única esperanza de la vacunación y ustedes insisten en negarles claro y preciso para terminar quieren silenciarnos pero les está saliendo mal al menos estamos logrando que salgan en la foto como lo que realmente son

sorprendió su iniciativa porque un partido que está en contra de las comunidades autónomas y

las coja el gobierno central el gobierno de españa me sorprende que usted inste al gobierno vasco a que elabore sus protocolos es que es una contradicción absoluta y por otra parte

porque protocolos hay y les recuerdo el protocolo que se difundió en los centros

a las propias semanas a raíz de conocer los hechos

señora ubera nosotros no tenemos ningún inconveniente ya le anuncio y

manifestado así en aprobar cualquier instrumento que nos permita el reglamento de esta cámara y que tengamos a nuestra disposición para llegar

en el asunto de las vacunaciones irregulares no tenemos ningún problema lo que queremos es que se sepa la verdad y se

le aseguro que esta parlamentaria realiza su labor de oposición contrastando la información y con absoluto rigor

si estuviera en la oposición y generar confianza señor tellería

del asunto y si una persona en este caso como la señora consejera ha quedado acreditado que no ha dicho la verdad porque no ha dicho la verdad

en el tema también de las vacunaciones y del proceso de vacunación la gestión de este gobierno está siendo absolutamente pésima y encima su responsabilidad tampoco la está ejerciendo cuando se entera de una vacunación irregular que se produce el día tres quince días después y porque se lo dice un medio de comunicación

su responsabilidad en que se envían cien viales y es un mero

no sabe nada o cuando hablamos de los registros cómo es posible que se hayan producido vacunaciones irregulares

eso es una actuación presuntamente delictiva estamos hablando de un acto médico que se tiene que registrar en el momento en que se produce qué pasa si a una persona no se registra

esos días y se registran otros días eso se ha conocido después eso qué conocimiento ha tenido el departamento de salud osakidetza todas esas cuestiones tienen que quedar absolutamente aclaradas y nosotros ya hemos dicho la consejera creemos que a día de hoy

por haber faltado a la verdad en sede parlamentaria y por ser la máxima responsable de la pésima gestión y desastrosa gestión en el proceso de vacunación es que esto no funciona es que esto no funciona y por lo tanto hay que dar un giro absoluto a estas cuestiones

así como que el gobierno vasco disponga de un plan específico mire señor rico usted me hablaba de una estrategia efectivamente hay una estrategia pero son recomendaciones que las elabora la comisión de salud pública junto con las comunidades autónomas sí pero son criterios

ahora se nos dice que la prioridad va a ser la edad

estamos defendiendo nuestras competencias es que tenemos un gobierno que está reclamando todo el día competencias y no es capaz de ejercer diligentemente y adecuadamente las suyas es que la planificación de lo que es la gestión de un proceso de vacunación corresponde a las comunidades autónomas en virtud de las competencias que tenemos atribuidas y eso es lo que el gobierno vasco no ha hecho no tenemos un plan que nos diga en qué orden va cada colectivo

les he afirmado y les he señalado en mi primera intervención que no se ha acabado con la vacunación de los profesionales de primera línea ayer cuando yo le pregunté a la consejera los mayores de ochenta años van por detrás de un grupo muy vulnerable

que están en sus domicilios personas con discapacidad de esas no sabemos nada

nada no ha dicho nada qué pasa con el personal también de las ambulancias tampoco sabemos cuándo se va a vacunar

farmacéuticos cuando estamos viendo que en comunidades vecinas se han vacunado a los farmacéuticos qué pasa en euskadi no le importa a este gobierno los farmacéuticos

las personas que están prestando servicios en las ambulancias estos profesionales también sanitarios

de ámbitos del espacio sociosanitario centros de día

qué pasa con los desequilibrios que hay y los distintos parece criterios que se están siguiendo en las distintas organizaciones sanitarias que lleva a que en una organización sanitaria se haya vacunado el ochenta por ciento y en otra no se llegue al cuatro por ciento dígame por qué en unas organizaciones sanitarias ya hay vacunados profesionales de atención primaria y en otras

creo que hay un hecho además que acabamos de conocer que corrobora

en osakidetza y en la ertzaintza por la falta de protección anticovid la falta de equipos de protección suficientes

es que lo acaba de corroborar y ratificar el tribunal supremo el gobierno vasco no ha estado a la altura y el gobierno vasco sigue sin estar a la altura

creemos que tiene que producirse un cambio en el departamento de sanidad eskerrik asko garrido andrea

no vamos a entrar en el terreno de la exageración de la hipérbole y de la teatralización que en ocasiones

también en la comisión de salud en algunos momentos para decir algo que es evidente para nosotros la planificación y la gestión de esta campaña de vacunación no se está haciendo bien no se está haciendo correctamente y no se está haciendo con la transparencia necesaria y sobre todo

voy a referirme a las y los profesionales de osakidetza

las y los primeros que han estado reclamando esta cuestión y diciendo este tipo de cosas por eso sobre todo y creo que

es acusar a la oposición no se ha hecho hoy con mi grupo es cierto pero acusar a la oposición de pretender debilitar a osakidetza de pretender dañar la imagen de osakidetza

a la gestión de un gobierno tengamos razón o no tengamos razón en nuestras críticas no se puede hacer eso porque osakidetza son miles de profesionales

la alta dirección directamente dependiente del gobierno vasco son miles de profesionales entre ellas trabajadoras que ni siquiera son de osakidetza que son de decenas de contratas de subcontratas

de la limpieza que además nos explicaron las condiciones lamentables en las que trabajan los incumplimientos por parte de la

sobre sus condiciones sobre su seguridad etcétera por lo tanto creo que jugar con lo de la imagen

las vacunaciones irregulares que se dieron en estos dos hospitales que las conocemos todas que son reconocidas por el gobierno que son reconocidas por las consejeras por la que ha dimitido un

no hubieran sido posibles si no hubiera habido una mala planificación y gestión de la vacunación que ha de ir modificándose porque si algo pusimos sobre la mesa esas dos cuestiones es que hubo

y eso es lo que nosotros pretendemos con la enmienda que hemos hecho a la iniciativa del grupo popular porque pensamos que

y no seguimos ni vamos a seguir ninguna estrategia con este asunto pensamos que se tienen que asumir responsabilidades porque no es en absoluto normal que llegasen esas quinientos y pico vacunas al hospital

y a la vez se nos diga que la planificación de cómo y a quiénes se vacuna está bien hecha por lo tanto

nuestra enmienda y sí que es verdad que nosotros no vamos a sumarnos a determinadas hipérboles porque el debate que se ha dado hoy a nosotros desde luego

no nos parece que haya sido no sé cómo ha dicho la señora martínez qué expresión

de estas cuestiones las veces que hagan falta esperpento creo que esa es la expresión que ha utilizado la señora martínez a mí me ha llamado la atención porque me puede gustar más o menos

pero yo el único esperpento que he visto en esta cámara es la presencia del partido vox eskerrik asko hernández

gracias señora presidenta venir aquí a repetir como preguntas

las mismas preguntas que ya fueron contestadas ayer y explicadas punto por punto en la comisión de salud yo creo que pone en evidencia que hay quienes

porque hoy se han formulado aquí cuestiones y agradezco el tono del representante de elkarrekin podemos que ayer fueron respondidas en la comisión

respondidas como si no se hubiera dado ninguna explicación y como si no se hubiera abordado de las dificultades

de vacunación y cómo poco a poco sin crear expectativas falsas se va ordenando miren subir aquí a decir que todo está

está perfectamente y que no hay ningún margen de mejora en nada y que la situación en euskadi

es tan ridículo una cosa como la otra y yo me niego a contribuir a un debate en esos términos

nosotros los socialistas tenemos absolutamente claro que este gobierno y cualquier gobierno

a las incertidumbres e inquietudes que puedan estar causando en la sociedad el proceso de vacunación y como primer objetivo este gobierno debe generar confianza en el proceso de vacunación pero este objetivo no lo olvidemos

de todas y cada una de las formaciones políticas que aquí nos sentamos lo repito los socialistas lo décimos con rotundidad comprensión contextualización o justificación con quienes no saben estar a la altura de la responsabilidad más grande que hayan tenido la oportunidad de gestionar cero les exigimos máxima ejemplaridad en este momento inédito de nuestra historia

lo décimos alto y claro e instamos al gobierno vasco a continuar exigiendo

y a que en caso de que se detecte cualquier irregularidad las clarifica y proceda a la depuración de responsabilidades eso es lo que se dice en nuestra enmienda porque eso también genera confianza saber que si alguien se salta la cola va a tener su castigo eso también genera confianza

que como saben existen hoy se lo recuerda hasta la señora garrido porque lo vuelvo a decir es que aquí hasta ayer

han dicho que no existía y como saben en estas estrategias y protocolos es donde se van desarrollando y estableciendo las prioridades de vacunación según vamos clarificando los escenarios

en la medida en que se van autorizando más vacunas en la medida en que sabemos el número de dosis que efectivamente nos llegan a través de la unión europea y también

que se van adoptando a través de la agencia europea del medicamento y que provoca determinadas adaptaciones como vimos con respecto a sacar una nueva dosis de los viales

y otra cuestión que quiero poner encima de la mesa es el valor de la cogobernanza se ha hecho una programación muy seria de la campaña de vacunación

y junto a todas las comunidades autónomas en el consejo interterritorial que en colaboración con los científicos han elaborado una estrategia que se va revisando continuamente para determinar los grupos de población que se deben vacunar

y ese es el valor del acuerdo que yo creo que es lo que debiera guiar todo este proceso y ese es el valor de la responsabilidad y si hablamos de responsabilidad política

esta es la primera que debiéramos tener los setenta y cinco parlamentarios y parlamentarias de esta cámara y es la que tenemos los representantes del grupo socialista generar confianza la estrategia y los protocolos están ahí las priorizaciones de grupos se van haciendo de común acuerdo en españa en base a criterios científicos y día a día

ayudamos a resolver las incertidumbres que este proceso

debe seguir siendo transparente y por eso instamos al gobierno vasco a continuar informando en la comisión de salud de las actualizaciones que requieran ser hechas en función de los tipos de vacunas y dosis disponibles y acabo en todo este proceso no lo duden la oportunidad de retratarnos yo solo espero que todos los grupos de esta cámara opten por asumir la responsabilidad que a todos y cada uno de nosotros nos toca para generar esa confianza
en la ciudadanía nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea mire señora garrido si el mayor problema

es que no escuchamos para entender que escuchamos para contestar lo suyo es peor usted ni escucha

ni siquiera quiere aprender usted solo contesta sin más le he hecho la larga reflexión sobre la necesidad de buscar la colaboración por no decir aquello de dejen de esparcir basura no es momento de trincheras más que nada por no pagar

y porque no soy de contar las cosas como en las redes sociales

que es a base de titulares que es el modelo que esta sociedad está adquiriendo y a algunos políticos

mire señora garrido lo suyo de estos días es confrontar sin piedad con el partido nacionalista vasco

pero esto tampoco me ha pillado por sorpresa porque no es nuevo su obsesión es hacerlo permanentemente

que estábamos confinados leí declaraciones suyas ya criticando al gobierno vasco por la falta de previsión con epi mascarillas que hoy lo ha vuelto a repetir

de la web parlamentaria y me encontré con un debate en comisión en el dos mil once

en el dos mil nueve al hilo de una pandemia anunciada por la oms ese mismo año por una gripe que algunos países afectaba gravemente al dos por ciento de los casos y progresaba a formas normales de neumonía se acuerda

de mascarillas sesenta millónes nos tocaba a veinticinco por ciudadano pues bien en aquella comisión de nuevo teatralizando una ficticia indignación y no estaba presente el consejero que ya el nuevo consejero era el señor bengoa

no me coja en falso fue una compra absolutamente desmesurada nos preocupa el despilfarro

de recursos públicos un retrato

porque mire ahora protesta porque no se había sido previsor porque no se vacuna como usted quiere a todo lo que le he dicho antes de la complejidad ahora mismo acaba de saltar la noticia que pfizer

esto obliga a cambiar y vendrá la señora consejera

no se puede saber cuándo le van a vacunar a usted ni a mí todavía no se puede saber porque claro ustedes se hacen eco de todas esas declaraciones que salen en los medios de comunicación

no imaginaba yo que había tanta gente en este país en primera línea

se reclama de primera línea o esencial y a los que más les hace falta que son los mayores de ochenta años como no están asociados ni sindicados

cuando son los que más falta les hace porque seguramente quieren empezar a salir a la calle

pero con la dificultad que hay pues es complejo mire ya le he dicho que la estrategia política que sigue es cosa suya faltaría más

pero que la que llevan siguiendo desde hace tiempo no es la mejor yo les he visto ir mermando

y lo que ocupaban desde aquí se ve muy bien lo que ocupan ahora lo que sí que le voy a decir

es que no voy a olvidar la falta de respeto y de educación que ha venido usted manteniendo estos días con la consejera

y con la práctica totalidad del departamento de salud mire el resto de mi grupo parlamentario podrá o no compartir esa opinión que en eso

pero la legislatura acaba de empezar va a ser larga y le avisó que yo no olvido

la que no me estaría liando ya en estos momentos desde las redes sociales

usted ha hecho pasar días insoportables a una médico de basurto que además es miembro del labi técnico porque sí cuando resulta que nadie y se lo han dicho nadie se vacunó los días cuatro cinco que esa médico se vacunó el día quince

refiriéndose a esa médico se vacunó sin corresponderle es una manera de mentir pues aplíquense lo que ustedes

porque se puede ser crítico pero faltar al respeto y a la educación a personas que no se lo merecen y que representan a las instituciones de todas y todos

sobrepasa las barreras que al menos yo entiendo razonables muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

no se confundan que no se confunda que no se trata de identificar enemigos ni adversarios se trata de asumir responsabilidades de cumplir de ser ejemplares de actuar con ejemplaridad y sí este debate

de acuerdo se trata de datos se trata de hechos otra cuestión es que no se quieran ver esos datos esos hechos y se mire al otro lado por eso estoy totalmente de acuerdo también que hay que generar

el grupo socialista retiraría la enmienda a la moción de vox dejando
la que hemos suscrito en el partido popular que lleva también ese punto y es más completo bale oso ondo eskerrik asko

presidenta señorías volvemos a traer los grupos nacionalista y socialistas vascos a esta cámara venezuela

con esta iniciativa sobre la situación de venezuela es evidente que no traemos nada nuevo ni nada original tampoco traemos

lo que vamos a decir aquí se sabe y se conoce lo que sí traemos hoy es la voluntad la determinación de llamar la atención de alzar la voz

que viven y padecen los ciudadanos y ciudadanas en venezuela

de su país venezuela es un país donde se vulneran a diario los derechos humanos donde se suceden las ejecuciones extrajudiciales las detenciones arbitrarias

de seguridad donde se ejerce la represión para silenciar la disidencia donde se viola la libertad de reunión y expresión venezuela es un país en el que

las medicinas los suministros médicos un país en el que escasea el agua la electricidad

han tenido que abandonarlo venezuela es noticia internacional por sus torturas con descargas eléctricas asfixia con bolsas de plástico

violencia sexual esto es lo que les espera a los detenidos

los derechos democráticos hay fiscalía tribunales defensor del pueblo pero efectivamente no actúan respecto a la violación de derechos humanos

es sustituido por tribunales militares en venezuela se persiguen a periodistas se censura a la prensa se multiplican los ciberataques

a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y para perpetuar esta situación se hicieron elecciones el pasado seis de diciembre elecciones sin garantías de libre participación de los partidos políticos

a dirigentes de la oposición elecciones en las que participó menos del veinticinco por ciento elecciones que no son representativas

democrática por la falta de pluralismo político pero esto viene de atrás y por eso también es necesario alzar la voz y multiplicar las denuncias como estamos haciendo hoy en este parlamento nicolás maduro está declarado en usurpación de poderes ejecutivos desde el quince de enero de dos mil diecinueve una presidencia a la que accedió de forma fraudulenta

y no reconocidas por la comunidad internacional por falta de garantías democráticas ahora una vez más la unión europea vuelve a verse obligada a no reconocer las últimas selecciones y a reclamar una solución política con la participación

y dirigentes venezolanos que articulen un proceso de transición un proceso pacífico integrador transparente que recupere la democracia las libertades los derechos la economía los suministros básicos los derechos sociales este es el interés de esta iniciativa

de la comunidad internacional lleve la solidaridad y la esperanza a los ciudadanos

que sepan los ciudadanos y ciudadanas de venezuela que desde el parlamento vasco les apoyamos en su objetivo de restablecer

hemen venezuela dejó de publicar desde hace años estadísticas oficiales y todos los datos que conocemos son estimaciones de organismos internacionales en base a indicadores propios

un desabastecimiento dramático de medicinas de productos higiénicos de primera necesidad de alimentos básicos que colocan a la población en una trágica situación en venezuela no hay agua no hay alimentos

sobra violencia por todas partes la población venezolana

de las mayores delincuencias comunes del mundo pero es que adicionalmente las fuerzas de seguridad dirigidas por nicolás maduro

sistemáticamente los derechos humanos según la oea entre dos mil catorce y dos mil veinte de dos mil catorce a dos mil veinte más de dieciocho mil cien asesinatos

por las fuerzas de seguridad del estado y los grupos paramilitares

eso es una media de diez asesinatos al día konparatzearren

y asesinatos además de todo esto

y han desaparecido setecientos veinticuatro personas que no sabemos

calabozos de la policía secreta de venezuela o eu una cuneta con un tiro en la cabeza y en este marco aterrador

a convocar el pasado seis de diciembre unas elecciones a la asamblea nacional los partidos opositores que conforman la mesa de unidad democrática decidieron por unanimidad no participar en estas elecciones primero

estaban intervenidos judicialmente yo quisiera aportar algunos datos para intentar entender la situación que vive la población de este país entre dos mil trece y dos mil veinte la actividad económica del país o sea

noventa y dos coma cuatro por ciento venezuela lleva cuarenta meses seguidos de hiperinflación

en este período en mil novecientos sesenta venezuela fue

certificado por la oms la organización mundial de la salud por haber erradicado la malaria de la mayor parte de su territorio

estamos peor que hace ochenta años porque se han dado seiscientos mil casos el mayor aumento de casos del mundo con seiscientos mil personas afectadas por la malaria

es que aquí asistimos a una destrucción sistemática de las poblaciones

con la explotación descomedida de las minas de oro y de diamantes

y son básicamente compañías rusas y chinas las que están llevando esa sobreexplotación

de armamento en un país que es de los más grandes

el cuarenta por ciento de la población cocina con leña el salario medio mensual

y los jubilados cobran de media dos dólares al mes el cincuenta y uno por ciento de los hogares se encuentra en una situación de pobreza estructural

pues decir que en venezuela desde hace tiempo el sistema nacional de salud ha hecho quiebra

ha bajado tres años y medio y eso se da únicamente en países que están

noventa y ocho cuando chávez ganó las elecciones por primera vez producía tres millónes de barriles de petróleo al día hoy en día veinte años más tarde y siendo venezuela una de las más grandes reservas del mundo de petróleo

al día por todo esto

denunciar la situación en venezuela y mire qué contradicción porque hace poco gustavo

declaró una de las pocas empresas del país que ha crecido es la bolsa y gustavo pulido

dolarizando la economía venezolana la única

esta desastrosa situación humanitaria es que maduro deje el país y se vaya y que se puedan organizar unas elecciones libres y democráticas

que estas elecciones no representan la voluntad de los venezolanos porque no se han cumplido los estándares mínimos

por eso nosotros vamos a apoyar esta como les decía anteriormente

proposición que ha hecho desde el partido nacionalista vasco y el partido socialista y nosotros hemos incluido

que se aprobara porque es importante por lo que voy a explicar a continuación pero antes de pasar a las elecciones yo creo que hay que recordar

es sencillamente que de aquellos polvos llegaron o vinieron estos lodos hay que hacer una breve radiografía permítanmelo y seré escueto de venezuela en las últimas décadas un país rico como recordaban otras personas en esta

naturales petrolíferos mineros de gas es decir todos recordamos o algunos recordaremos el famoso give me two

de muchos venezolanos que iban de venezuela a miami con la riqueza que tenía venezuela y les parecía tan barato

pues está hoy esa venezuela en la bancarrota arruinada económicamente y arruinada en las libertades

los respetos a los derechos humanos desde que llegó entre comillas el salvador chávez a arreglar todo lo de venezuela

que hay que recordarle militar golpista que hizo una sonada y fracasó en su sonada

por supuesto que sí pero elegido democráticamente por la ciudadanía venezolana chávez creó

lo recordarán un partido político y al llegar al poder cambió absolutamente todo la constitución la democracia y pasaron a ser una

cuando llegó al poder llegó para controlar todos los órganos y ámbitos del poder es decir el legislativo el ejecutivo el judicial llegó al

en los últimos días aquí lo podemos además traer a nuestro país controlar los medios de comunicación y expulsar a periodistas o que desaparecieran periodistas de venezuela controlar y colocar a dos siervas del régimen al frente del consejo electoral nacional las conozco muy bien

y ahora indira alfonzo para controlar como les decía y manipular todas las elecciones

en venezuela durante este tiempo y además eliminar al estilo putin a cualquier oponente que se presente

de la oposición y ahí están los casos del señor rosales del señor capriles del señor leopoldo lópez de la internacional socialista

de mi buen amigo el alcalde de caracas el señor ledesma y ahora

maduro tras aparecérsele el famoso pajarito de chávez los mismos pasos que hizo su antecesor pues bien ante

llegamos al seis de diciembre a las pasadas elecciones maduro convocó unas elecciones

o fake elections como se dice ahora y por tanto

es un usurpador en el poder afortunadamente

en la comunidad internacional de los demócratas reconoce la falsedad y el vicio de origen de las fraudulentas elecciones del seis de diciembre pasado y por ello

y la honestidad de los valores democráticos aconsejan para no caer en un vacío de poder el reconocimiento constitucional de la asamblea nacional del dos mil quince

guaidó como hemos presentado el grupo partido popular y ciudadanos

porque hasta que se reconozcan unos nuevos comicios transparentes inclusivos homologables y con plena participación de todos los candidatos

no será posible sin duda alguna hablar de unas elecciones libres y democráticas en venezuela lamentablemente yo ya les prevengo a todos ustedes les prevengo de una cosa que esto no va a pasar no va a pasar nunca con maduro

porque contrariamente señorías a lo que piensan muchos ingenuos

va nunca a negociar una salida democrática porque sabe que siempre perderían unas elecciones libres y transparentes y digo más el régimen de maduro ha robado tanto ha delinquido tanto ha narcotraficado tanto que la única salida posible está ante el tribunal penal internacional de la haya para ese régimen

con la intervención e intermediación de la santa sede o de los tres

donde los promovió noruega o el grupo internacional de contacto últimamente recordábamos enviando una misión semiclandestina a caracas el pasado mes de octubre resultado de todo eso que les estoy diciendo de todos esos procesos de diálogo ninguno nulo absolutamente nulo y hay que decirlo el régimen solo busca ganar tiempo y una cierta legitimidad internacional

democráticas señorías venezuela no es un país en guerra y el éxodo que ha generado y genera la crisis

la crisis sanitaria la crisis humanitaria está alcanzando los más de cinco millónes de personas

desplazadas y exiliadas y con unas perspectivas todos lo sabemos aún más dramáticas sí cabe unas cifras similares fíjense a la guerra civil de siria y que se suma un número de víctimas hay que recordarlo también en venezuela de varios cientos de miles

instigada y practicada por el estado chavista como han dicho las naciones unidas que acusan

naciones unidas desde la onu de haber cometido crímenes

la humanidad fíjense termino ya señoría

con ello termino gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó por eso

europea haremos todo lo posible por ayudar a todos esos venezolanos

se quite el yugo de la oposición de este gobierno lamentable bolivariano
de maduro muchísimas gracias señora presidenta eskerrik asko iturgaiz jauna

en algunas cosas podremos estar de acuerdo y una de ellas es en la primera parte de la intervención del señor

los mismos términos como si no hubiera cambiado nada en la realidad de

se sabe se siente que no hay ningún interés en querer llegar a un acuerdo amplio con este

como creo que no es ninguna sorpresa votaremos que no a la proposición no de ley

hace al menos cinco años una grave crisis política una grave crisis económica que exacerba además la crisis política

características estructurales de la economía venezolana en el monocultivo del petróleo y en la crisis de precios que hubo hace unos años

esa crisis por las sanciones económicas y bloqueo impuesto de forma unilateral y además de forma ilegal por los estados unidos y también por la unión europea porque ya que el señor iturgaiz ha hablado mucho de derecho internacional

adoptar el consejo de seguridad de naciones unidas que no ha adoptado

olvidar todos ellos hemos expresado nuestro rechazo a cualquier vulneración de los derechos humanos

del mundo en cuanto al tema de las elecciones que es en lo que se centraba la proposición no ley las elecciones las convoca el consejo nacional electoral nicolás maduro

ninguna capacidad de convocar ni de poner la fecha y además se hace cuando caducan los cinco años de mandato del anterior presidente en la asamblea nacional el señor

han participado los partidos que han querido en esas elecciones por parte de los sectores

la oposición chavista crítica encabezada por el partido comunista de venezuela y por parte de la oposición quienes han querido participar han participado como ha sido acción democrática

de partidos la abstención muy grande una participación del treinta y dos por ciento no puede ser un buen dato ni en venezuela ni lugar del mundo qué refleja en nuestra opinión esa participación una crisis política en el tiempo una crisis de legitimidad del gobierno

por parte de la oposición por cierto muy dividida un agotamiento social por la crisis económica y además una abstención que incluye también los que por desgracia han tenido que salir de venezuela por la situación económica que

millónes de personas y por si no fuera poco todo este contexto evidentemente

pero no desconocemos unas elecciones por ejemplo en portugal las presidenciales con una participación del treinta y ocho por ciento o no desconocemos unas elecciones europeas con unas cifras de participación del veintinueve por ciento en croacia el treinta por ciento

checa reflejan esos niveles de participación problemas de los sistemas políticos pero en ningún momento desconocemos los procesos electorales observación electoral han ido quienes han querido a la unión europea se le invitó y el señor borrell que por cierto lleva unos meses con bastante mala pata dijo que no

o institucionales de treinta y cuatro países ahí están los datos por supuesto desde elkarrekin podemos izquierda unida aunque no tenemos evidente potestad

elegida en las elecciones del mes de diciembre igual que reconocimos la asamblea nacional saliente de hace cinco años y que dio lugar a la presidencia de la asamblea nacional

igual que reconocemos las elecciones de dos mil dieciocho donde contra otros tres o cuatro candidatos con los más

internacional europeo y luego podremos reconocer y podremos dejar de reconocer a la asamblea nacional pero yo les invitaría a pasarse por la embajada de venezuela en españa

lo demás son fuegos de artificio además no podrán reprochar ni a esta coalición ni históricamente a mi formación política izquierda unida que no haya reconocido todas y cada una de las elecciones habidas en venezuela

y también por cierto de condenar el golpe de estado del año

chávez creo que todos los grupos de esta cámara no podemos decir lo mismo y el suyo señor iturgaiz por cierto

participante activo de ese golpe de estado y además rechazamos todas las vías violentas que un sector un sector porque no es toda la oposición de la oposición venezolana

al gobierno y por supuesto condenamos las acciones del señor leopoldo lópez hablan en su iniciativa de hablar con todos para una transición de la que por cierto excluyen excluyen expresamente en su iniciativa a la fuerza mayoritaria

en cuanto a formaciones políticas del gobierno sí sí lo hacen rara manera de hablar con todos

reconocimiento del otro cosa que no suele suceder por parte de un sector muy amplio de la oposición no por toda la oposición acuerdos para mejorar las condiciones de vida

orquestadas desde fuera ni va a pasar

ni pasará y hablaba de las sanciones voy a tener poco tiempo para hablar de ello

internacional pero ustedes en su iniciativa y tampoco el partido popular ciudadanos hacen ni una sola ni una sola mención a ellas las sanciones son fundamentales para contribuir que los ingresos fiscales del estado hayan pasado cincuenta mil millónes de dólares a quinientos millónes de dólares en un año y esto lo digo el señor iturgaiz

la que dice que las medidas estadounidenses que incluyen por ejemplo congelar los recursos del pueblo venezolano que están en cuentas en estados unidos de pdvsa

supone el bloqueo total de la economía por parte de estados unidos en el año dos mil diecinueve otorgar a juan guaidó el control sobre los activos y el dinero venezolano en estados unidos por cierto

qué objetivo tienen unas sanciones que prohíben la importación de alimentos a un estado soberano

acabar con la confianza del pueblo de venezuela y que tengan unas condiciones peores para que quiera cambiar el gobierno eso es lo que se está haciendo desde fuera y eso es lo que estados unidos y la unión europea han hecho todavía más de diez mil millónes de dólares del estado venezolano bloqueados en cuentas internacionales que las ha solicitado con un

y siguen bloqueadas y esto afecta evidentemente

a los programas sociales que benefician al pueblo al fin al cabo

las únicas vacunas o saben cuáles son las únicas vacunas que no están en ningún país de américa latina en estos momentos las de la unión europea y las de estados unidos saben las únicas vacunas que se están distribuyendo ahora mismo en américa latina

y una fabricada en la india y a partir de marzo la cubana

que no están sabiendo ver porque esto no solo son gobiernos de izquierdas no son gobiernos progresistas son gobiernos de derechas los que

y saben quién también denuncia las sanciones pues la confebask venezolana fedecámaras fedecámaras una organización que promovió el golpe de estado de dos mil dos está denunciando y por aquí lo tengo

nos impiden comerciar con empresas en el extranjero por tanto no podemos hablar de diálogo si por la otra parte por la parte de estados unidos y la unión europea se imponen sanciones a un país que es soberano nos guste más

menos jamás verán en nuestra formación

unilaterales a ningún país por tanto reitero nuestro reconocimiento a las elecciones del mes de diciembre nuestra condena más rotunda a las sanciones y también a las que las

que la oposición tiene tres estrategias diferentes y que ellos mismos tendrán que ordenarse que respaldamos también a la oposición que se presenta a las elecciones y a la oposición como la de enrique capriles que también está dispuesta a hacer el diálogo con el gobierno

en el extranjero y vuelvo a reiterar nuestra

y una labor que respaldamos del presidente zapatero militante del partido socialista obrero español que firma esta proposición no de ley que ha participado como mediador de las elecciones y también promotor del diálogo

no cuente con nosotros eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

rechaza los comicios no reconoce el resultado la dictadura o la deriva dictatorial llama a todas las fuerzas políticas y sociales bueno y pide el apoyo a todas las instituciones ze proposamen ekarri diguzue hona y ya no solo por los lazos históricos que

euskal herria con venezuela desde euskal herria bildu creemos y desde un profundo internacionalismo que lo que nos corresponde es acompañar

toda nuestra disposición para resolver la crisis multidimensional que afecta a toda la humanidad y también al pueblo venezuela

de la criminal política de sanciones que imponen algunos países a venezuela estados unidos lleva aplicando sanciones contra venezuela desde el dos mil cinco

cuando obama declaró venezuela como amenaza para la seguridad nacional en dos mil diecisiete

y embargo económicos han ido endureciéndose entre los bancos de estados unidos reino unido y portugal los activos congelados a venezuela ascienden a seis mil millónes de dólares en nombre

ustedes le niegan a venezuela poder usar sus propios activos y ustedes se atreven a venir aquí a hablar de situación económica del hambre de la migración venezolana cuando a pies juntillas están amparando la cruel política estadounidense la de trump

van a seguir ustedes con la misma política honek ezin du honela jarraitu

relatora especial que ya ha sido mencionada únicamente por elkarrekin podemos izquierda unida y curiosamente ni por el pnv

cita propuestas concretas para empezar a dar la vuelta a la situación tan dramática que vive venezuela y querría acabar con estas de manera constructiva

sus ciudadanos y ciudadanas y empresas afectan a las personas de venezuela y de fuera de su territorio también tanto en el sector público como en el privado

las mujeres los niños las personas con diversidad funcional o enfermedades crónicas o graves son las más afectadas con respecto

incluidos derechos civiles políticos económicos sociales y culturales ella recuerda a las partes su obligación en virtud de la carta de las naciones unidas

de igualdad soberana y solución pacífica de las controversias internacionales y pide a todos los estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios de derecho internacional

y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del banco central de venezuela para adquirir medicamentos alimentos equipos médicos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias subraya la relatora que el gobierno de venezuela

una resolución que promueva más democracia más soberanía

por y desde venezuela y para todas eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzunen txandara pasatuko gara

sí señora presidenta desde el escaño porque solamente quiero hacer dos puntualizaciones todo lo

en la iniciativa se trataba en este punto de llamar la atención sobre una situación que persiste y que es muy dura y difícil para venezuela

logrado se trata de que no caiga en el olvido

los venezolanos tengan el aliento de la comunidad internacional y en ella nos incluimos como parlamento vasco pero sí quería hacer dos puntualizaciones señor iturgaiz en relación con su enmienda efectivamente no hemos contemplado la enmienda porque es cierto que el señor guaidó ha jugado un papel destacado en un momento

de la situación política en venezuela pero yo creo que hoy la situación está en otros términos y está en los términos en los que plantea

unión europea cuando dice que la unión europea ya hace un llamamiento a las autoridades y a los dirigentes de venezuela para que antepongan

para iniciar un proceso de transición dirigido por venezuela con el fin de dar una solución pacífica integradora y duradera

política bueno digamos que hoy los términos de cómo se tiene que hacer esa transición

no tienen un protagonista definido o claro lo que se pretende es que sea el conjunto

autoridades y de los dirigentes y grupos políticos de venezuela los que lo resuelvan y precisamente eso también permite

al señor martínez lo dice la resolución de la unión europea y lo décimos también nosotros en nuestra iniciativa

diálogo se construya entre todos y lo especifica además tanto una iniciativa como la otra queremos que se construya

y queremos que se haga en venezuela por lo tanto no hay ninguna idea de que el diálogo sea impuesto o de que alguien ocupe el espacio de protagonismo que les corresponde a los venezolanos en su futuro nuestra reclamación precisamente yo creo que

fundamental más allá de llamar la atención por la situación tan dramática que se vive allí lo más sustantivo de nuestra posición de nuestra declaración

trabajar apoyar sumar esfuerzos para que

con sus autoridades y fuerzas políticas se pueda construir ese proceso de transición que lleve a unas elecciones libres y democráticas y que

y terminar con la violación de los derechos humanos muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

dónde estaba nuestra voluntad de acuerdo amplio pero no sé dónde hace falta

condenar una dictadura y para denunciar sistemáticamente las vulneraciones de derechos humanos y tampoco se puede echar la culpa a países terceros cuando

ha tenido absolutamente todo entre sus manos las instituciones el barril de petróleo a ciento cuarenta y siete dólares en la época de chávez ciento cuarenta y siete

y no ha arreglado ni un solo problema estructural de venezuela

me extraña que partidos o coaliciones como eh bildu y elkarrekin podemos

supuestamente son de izquierdas y a favor del pueblo del progreso social no se

maduro el pueblo venezolano no tiene para cuidarse

no respeta los derechos humanos nik hemen ekarri nahi nuke

supuestamente roosevelt te hubiera dicho hablando de anastasio somoza

primer dictador de la familia somoza que era un hijo de p pero era nuestro hijo de p pues a mí me parece que a elkarrekin podemos

lo mismo que nicolás maduro es un corrupto es un dictador

yo creo que ciertamente también hipocresía a la hora de condenar un dictador

porque nos pueden convencer de cualquier violación de derechos humanos en cualquier parte del mundo

no se atreven a hacer lo mismo al revés y esto no es una revolución bolivariana esto es un insulto a simón bolívar chávez ganó las elecciones de mil novecientos noventa y ocho porque hizo

de democracia inclusiva de respeto a los derechos sociales y humanos pero engañó engañó y traicionó a su pueblo y nicolás maduro ya ni les cuento desde el dos mil catorce

y desde luego como esto sea su modelo de progreso pues no vamos a ir muy lejos juntos hoy en día maduro resiste pero no gobierna el país y si está es gracias a los militares que ha colocado en todas las empresas importantes del país

gran capacidad de gasto y sobre todo los militares gran capacidad de robo están saqueando venezuela

lo que sí les puedo decir es que venezuela tardará décadas en recuperarse y en recuperar un mínimo de bienestar social

antes de que esto pueda ser posible eta

ezin du onartu y por eso pedimos a este parlamento vasco y a todas las fuerzas políticas tanto sociales y políticas tanto en venezuela como en europa que apoyen una transición pacífica y que se respeten los derechos humanos y en cuanto a la enmienda del partido popular simplemente decirles que nosotros creemos

desde aquí pero apoyamos el papel de opositor

legebiltzarburu andrea me va a permitir que comience con una

con un comentario a la representante de bildu usted decía que

incluso le molesta yo creo que le molesta que hablemos de venezuela en cambio aquí ustedes como otros grupos políticos con todo el respeto lógicamente ustedes aquí pueden traer o podemos hablar

o de otros lugares del planeta y no tienen empacho en traer iniciativas sobre esos lugares y aplauden ustedes en alegre biribilketa

es muy grande por lo tanto ustedes también tendrán que entender que aquí podamos recordar lo que está pasando en venezuela cuando además hay una falta de libertades y de derechos humanos en venezuela como se está viviendo en estos momentos

que comenzaba diciéndonos que la crisis de venezuela es la crisis del petróleo hombre

pero no haga trampas en el solitario es una crisis y es una crisis

de derechos humanos y es una crisis de libertades y de derechos humanos porque si hubiera una crisis

qué función tendrían entonces en estos momentos países como noruega canadá los estados unidos arabia saudí

curiosamente a venezuela no será por la responsabilidad política económica social de sus amigos los que están gobernando en venezuela yo le quiero decir además

tiene la suerte y yo usted y yo desde las antípodas en ese discurso tenemos la suerte los dos de que hemos venido

y que cuando hacemos un discurso sobre este asunto vamos a poder marcharnos los dos

amigo mío y usted lo sabe ese es el gran problema porque hay algunos que por hacer este discurso que usted hace aquí

en venezuela especialmente lógicamente en la oposición

imposible o se les mata se les mata por ir en contra del régimen y dígaselo

a maría corina machado a líderes de la oposición que por liderar la oposición

están machacados en venezuela como tantas y tantas personas que están en la oposición en venezuela eso lo he vivido yo yo también he sido en muchas ocasiones no sé cuántas ha sido usted yo no me muevo en las mercedes chacao o chacaíto

usted también me alegro porque hay que ver las dificultades y las diversidades de caracas

y que tiene venezuela o a cotiza por poner un ejemplo o varios

y yo tengo el honor y tengo que decirlo así de tener una condecoración de chávez

retenido y expulsado de venezuela a mí

peor suerte le mandaron a sao paulo porque era el primer avión que salía de caracas a mí era el de madrid

en ese país simplemente por decir las cosas que digo hoy aquí simplemente por esas cosas

de la unión europea y estamos aforados de la unión europea fíjense los que se quedan en venezuela cómo pueden estar pasando

en venezuela quiero decirle también usted me comentaba anteriormente sobre el dinero que

ustedes sabrán dónde está determinado dinero y determinado oro pregúntele a su amiga delcy rodríguez que se pasea con maletas

con oro venezolano por aeropuertos muy cercanos muy cercanitos a aquí no no sí sí usted señala allí ya ya pues bueno pero ustedes también sabrán se lo pueden preguntar

delcy rodríguez mire yo quiero decirle este es un planteamiento señor

a los dos donde los bloques que apoyan usted piense un poco mire el

está la unión europea el reino unido japón canadá australia los estados unidos biden eh también los de trump pero también los de biden ustedes

por bielorrusia por iran por nicaragua por cuba

es la diferencia y en eso conlleva lo que le decía al comienzo

respetar los derechos humanos y las libertades en un país y no respetarlas y atemorizar machacar y aniquilar a la sociedad

eskerrik asko señor prieto por qué no apoyamos esto pues porque

económico como el que por cierto la patronal está haciendo ahora y el gobierno está haciendo con la patronal allí en venezuela pero usted se imagina que

hubiera hecho una declaración escrita citando el estado español

pacífica y política por el conflicto de cataluña qué hubieran dicho ustedes que se meta en sus asuntos que no ingiera en la política interna de

seguramente hubieran dicho eso y además

que hagan falta pero nunca con ideas preconcebidas ni con planes preconcebidos desde fuera que llevan hacia transiciones que supongan el señor aguirre decía no los venezolanos son los que tienen que elegir a su presidente pero de momento usted ya ha dicho no pero maduro fuera maduro fuera del país ni siquiera le da el derecho a vivir

con qué competencias la vulneración de derechos humanos lo vuelvo a decir aquí

que en bielorrusia que en rusia que en cataluña o denunciar el encarcelamiento de un rapero en el español o la brutalidad policial

o ayer en madrid o antes de ayer en cataluña a la vez

los disturbios claro todas todas pero todas sin una condicionalidad nosotros usted no está en el intergrupo de colombia o en el del sahara cuando hacemos una declaración

las vulneraciones de derechos humanos que se hayan producido concretas o generales

en ningún caso y a mí me gustaría tener la capacidad

a iván duque pero en ningún caso décimos que ese señor

dictadura con la que en encima tenemos relaciones no décimos eso

de cambios políticos en regímenes políticos que nos gusten más o menos yo no tengo ningún modelo que quiera exportar aquí

no quiero no lo quiero ninguno quiero hacer mi proyecto político en euskadi y en el estado español pero no me caricaturice con que nosotros queremos

supuestamente no lo sé lo desconozco lo estudiaremos y si me puede pasar documentación le agradecería que están cometiendo

la pasada legislatura y no solo aquí en el congreso en el parlamento europeo y también con las ong a nivel internacional luchamos para que haya un tratado vinculante de empresas y derechos humanos para las petroleras chinas y rusas y para iberdrola para todas lo que pasa

a una empresa vasca no no no todas son ejemplares

todas las prácticas y malas prácticas de todas las empresas me da igual

o de bruselas me da exactamente igual por tanto reitero

las utilizamos con fines de cambios de regímenes políticos y usted ha dicho todos

unas nuevas elecciones que por cierto tocan si no me equivoco en dos mil veintitrés a mitad de mandato por cierto una figura que aquí no existe

del mandato lo podíamos incorporar en la reforma del estatuto de autonomía para que incluso de cualquier diputado o diputada pueda ser sometido en base

que se haga pero todos y su iniciativa con su explicación muchísimo menos no es inclusiva y no busca un diálogo sincero

seguramente en el fondo estaremos todos de acuerdo en que la situación económica es muy grave y que hay que solucionarla pero por supuesto tampoco incluyen el tema de los que es fundamental para acabar con la situación económica

si la transacción que hemos firmado es

que sustentan al gobierno se me puede antojar

que la fuesen a respaldar así sin más pero desde luego lo que sí estamos convencidos es que esta iniciativa que propone la señora ubera era absolutamente negociable creemos que era una iniciativa en términos propositivos

podríamos haber hablado y sobre la que se podían haber llegado a acuerdos porque además pues en alguna ocasión anterior sobre cuestiones similares hemos llegado también a acuerdos nosotros con

ese espíritu también de llegar a acuerdos hemos planteado planteamos una enmienda

más importantes partiendo del acuerdo con la iniciativa original

tan clara y estábamos pues desde luego abiertos a hablar

con todos los grupos nosotros lo hemos trasladado a la señora ubera qué cambios

en la propuesta de transacción que nos hizo y antes de que digo porque en otras ocasiones ha pasado antes de que nadie me diga que no le he llamado creo que el relato tiene que ser

nos ha hecho una propuesta de transacción creo a todos los grupos

que apoyan al gobierno nosotros hemos respondido con nuestras aportaciones y abiertos a hablar con todos los grupos y por lo que sé o hasta donde yo sé

que ni han respondido a esa propuesta lo digo

yo no les he llamado porque entre cruzar mensajes cuando se está negociando sobre una iniciativa original pues desde luego me parece

un mal método y lo digo también porque se decía antes que la gente cuando pase la pandemia tendrá memoria y es verdad es verdad

y creo que son los grupos que sostienen al gobierno los que de manera muy explícita y muy abierta no tenían ninguna voluntad de hablar y supongo que eso también

qué es lo que proponíamos nosotros hacíamos incidencia sobre una cuestión sobre la que hemos venido llamando la atención

septiembre al departamento porque nos parece que de alguna manera es un poco

el talón de aquiles de la política de prevención respecto al virus

este gobierno que es la cuestión del

la cuestión de los rastreos en cuanto a metodología y en cuanto a recursos y es verdad y ayer

en la comisión sobre esta cuestión es verdad que ha habido cambios y algunos tienen que ver con algunos acuerdos que se han alcanzado en esta cámara

y ha habido cambios también en cuanto a la metodología y eso es bueno y nosotros vamos a reconocer que algunos de esos cambios han dado resultados positivos y por eso

con otros desde luego con los que consultamos nosotros nos dicen que hay bastante margen de mejora en esta cuestión y que tenemos ejemplos importantes en otros países

bastante lejanos en cuanto a metodología desde luego en cuanto a recursos también por eso nosotros proponíamos en nuestra enmienda original un cambio en la metodología pero en el acuerdo al que hemos alcanzado una mejora

en la estrategia de rastreo y luego los recursos sobre todo por una cosa

lo ha dicho la señora ubera y yo comparto pues para que no supongan las afecciones que están suponiendo

y que creemos que efectivamente después de un año pues el gobierno y el departamento tiene la capacidad suficiente

así y finalmente

en nuestro primer párrafo de nuestra enmienda y que va incluida en la transacción que tiene que ver con los cribados específicos

que nosotros no lo vemos tan claro de la iniciativa original y que se incluye en la transacción porque tampoco tenemos inconveniente en que se incluya pero es verdad que los cribados masivos pues están siendo de una

eficiencia pero en cambio los cribados selectivos especialmente y es donde nosotros queríamos incidir en determinados colectivos por el lugar que ocupan en la vamos a llamarlo así cadena de transmisión del virus hacia las personas o colectivos más vulnerables

muy eficiente en cuanto a prevención y también

incluíamos esto que es la parte que quiero destacar de nuestra enmienda que va incluida en la transacción y sobre la que yo creo que se podría hablar porque creo que el gobierno

es que estos cribados específicos en determinados ámbitos importantes no se han venido haciendo como se debería haciendo por qué se tienen que hacer con una alta frecuencia y por lo que sabemos

nosotros hacemos una enmienda y llegamos a un acuerdo de carácter absolutamente propositivo

de poder hablar y llegar a acuerdos sobre esta cuestión que en este momento pues a todas y a todos nos tiene absolutamente

seguimos debatiendo iniciativas en relación al covid lo que evidencia que este gobierno el gobierno vasco pues no está haciendo las cosas bien o hay muchos aspectos susceptibles de mejora

aspectos en los que se producen deficiencias y este grupo como no podía ser de otra forma ha presentado esta

y en donde pueden estar las necesidades actualmente en relación a la gestión de la pandemia y sobre todo teniendo en cuenta pues como decía las necesidades existentes en diversos ámbitos por lo tanto

con las personas que están trabajando día a día en este asunto creo que es importante y lo decía anteriormente digo ya sé que el partido nacionalista vasco y el partido socialista tienen su mayoría y que bueno pues posiblemente saldrá su enmienda a la totalidad como viene sucediendo

plenos y especialmente en esta cuestión pero quiero también recordar el pronunciamiento del tribunal supremo que hemos conocido esta mañana que ratifica el pronunciamiento anterior en una instancia inferior el tribunal superior de justicia del país vasco señalando que

de determinados colectivos que están asistiendo en primera línea o prestando su ayuda y si asistencia en primera línea a la lucha contra la pandemia como es

y los sanitarios creo que sí es importante ya hemos leído la valoración del gobierno vasco que la respeta pero que no la comparte

judiciales pues están ahí y obviamente hay que respetarlas como decía apoyaremos la enmienda de transacción

que es la existencia de una planificación de un calendario de un plan que no conocemos a día de hoy lo decía en mi moción anteriormente creo que es importante que

por parte de la comisión nacional de salud pública y las comunidades autónomas y el consejo interterritorial las recomendaciones pueden

de criterio que no sabemos muchas veces a qué obedece y las ciudadanías sí que asistimos un tanto perplejos

también sus razones para hacerlo así pero sí que es cierto que nosotros centramos la crítica en este caso en el gobierno vasco porque entendemos

pues como decía anteriormente en la moción que he presentado de este grupo creemos que las cosas no se están haciendo bien y que hay múltiples deficiencias por eso hacía referencia a la necesidad de un plan que establezca

el conjunto de los colectivos decía antes el señor tellería pero es que

pues me vacunaré presumiblemente las últimas en esta comunidad autónoma pero yo creo que yo con mis circunstancias o cualquiera otra persona una persona que pueda estar con una enfermedad crónica o una persona que pueda ser de riesgo cualquier persona tiene por lo menos

ya sabemos que hay distintos tipos de vacunas y cada una se puede aplicar o tiene potenciales destinatarios en un determinado colectivo pero es que todo este

como está sucediendo es impresionante y luego lo que sucede es que los ciudadanos asistimos de alguna forma y le hablo como ciudadano no le hablo como representante

y ciudadanos en esta cámara sino que los ciudadanos asistimos perplejos a todos estos cambios de criterios o muchas veces la falta mejor dicho de criterios que estamos viendo en la gestión del proceso de vacunación en relación como decía

que se establezca ya ese plan es lo que hemos pedido en nuestra moción anterior

el punto en el que se centra la iniciativa del grupo proponente todo lo que tiene que ver con los equipos de rastreo no reforzarlos y mejorar también la detección temprana de los focos en donde se puedan estar produciendo

para identificar las posibles fuentes de infección de la persona contagiada creo que es importante también prestar una atención una especial atención

y finalmente creo que la motivación de esta iniciativa como

después de las navidades y yo lo decía ayer también

que más allá de que se tienda a culpabilizar a algún sector yo creo que también hay que hacer o el gobierno vasco debería hacer una reflexión una reflexión porque fue el gobierno vasco el que también bueno pues permitió que las medidas adoptadas antes de la navidad pues se aliviaban de cierta forma

los repuntes como consecuencia de la navidad han venido directamente derivados y así lo dicen los diversos estudios que hay a nivel nacional

mayor esfuerzo en las labores de concienciación y sensibilización

familiar y de los contactos sociales y luego yo creo que este gobierno es algo que no está haciendo cuando se adoptan medidas drásticas que afectan claramente a un sector y que limitan su actividad durante un periodo de tiempo tan largo

estas medidas restrictivas de una forma directa lo que corresponde al gobierno vasco es ya no solo justificar debidamente esas

u otros también me estoy refiriendo al ámbito del comercio al ámbito de los autónomos en general

diseñar auténticos planes de rescate y las ayudas aquí han sido absolutamente insuficientes o sea lo que no se le puede que yo no cuestiono la medida para nada y este grupo no la cuestiona si hay que cerrar hay que cerrar

según hemos conocido en el auto provisional del tribunal superior de justicia del país vasco en donde por cierto las alegaciones creo que igual tampoco el gobierno vasco hizo muy bien los deberes porque las alegaciones de la hostelería debieron ser sesenta folios y el gobierno vasco

que no había razones suficientes pero fueron bastante en folios por lo que la información que me ha llegado bastante más escasas y no llegando a los cinco

anécdota aparte sí que creo que señora consejera

en estos debates como no podía ser de otra forma entiendo también

que ustedes cuando adoptan una medida de carácter tan restrictivo que obliga a un determinado sector a una determinada actividad a bajar la persiana o sea lo que no se le puede

en ese sentido pues las ayudas que han arbitrado y que han puesto en marcha son absolutamente insuficientes bueno en definitiva creo que el acuerdo que se aprueba hoy

que seguramente los grupos que apoyan al gobierno voten que no es importante para poner el énfasis en cuestiones que creo que son susceptibles de mejora en el ámbito

gracias señora presidenta yo lo decía en el anterior debate creo que cuando

en la realidad nos hacemos un flaco favor y a mí me da la sensación de que se traen debates repetidos cuestiones que ya hemos abordado incluso en algunas en las que hemos acordado

políticas y que se han llevado a cabo y que se vuelven a traer como si no se hubiera realizado nada yo no voy a decir qué es lo que hace cada grupo con sus iniciativas cada uno sabrá cómo gasta el cupo de iniciativas que tiene pero a mí lo que sí me preocupa es que cuando se traen luego estos debates se trate de obviar

pues vienen incluso a contradecir aquellos datos e informes que tenemos todos los grupos

del parlamento pero es que a nosotros incluso ya nos llega el correo electrónico directamente como respuesta a solicitud de información

es cuando incluso son los propios grupos que han hecho esas solicitudes de información documentada y que han recibido

los que vuelven a traer aquí esa iniciativa o no esperando a que llegue la respuesta es decir se pregunta por ejemplo al gobierno qué se va a hacer con respecto a tal y se traiga una iniciativa diciendo qué es lo que se tiene que hacer

no vienen bien al discurso que se quiere plantear

en comisión que la pandemia nos llegó hace prácticamente un año sin libro de instrucciones y nos llegó sin libro de instrucciones a todos a los que estamos en los gobiernos a los que están en la oposición a quienes están en los servicios sanitarios

otro ámbito y el gobierno vasco como cualquier gobierno como cualquier gobierno lo que hace es adoptar las medidas que se valoran

análisis de expertos en estas materias porque a veces se nos olvida pero ni ustedes ni yo somos expertos epidemiólogos

pero creo que aquí tampoco hay ningún experto epidemiólogo y esta no es una tarea sencilla

de decisiones la haga el gobierno de un color político la haga un gobierno de otro inciden muchas circunstancias

y que van cambiando con el tiempo y claro que existen márgenes de mejora pero es que ustedes tratan de presuponer

no aborda ni atiende a esos márgenes de mejora según se van detectando

y entiendo que cualquier gobierno está en la búsqueda de esos márgenes de mejora para hacer frente mejor a esta situación de pandemia de una forma constante

existe de hecho yo no sé cuántos

con comparecencias explicando esa estrategia sanitaria y es que se hace de una forma transparente se dan los datos cuando se solicitan y además se viene aquí

oportunas pero lo que no podemos perder de vista es que esta estrategia además se va adaptando continuamente y ojo porque esto también es una cuestión importante aquí muchas veces se dice que se hagan cambios pero también cuando luego se hacen cambios

que esos cambios vienen motivados porque el anterior era un caos y no es verdad es que no es cierto esos cambios vienen motivados porque vamos conociendo mejor

claro y esos cambios se hacen en todas las administraciones en todos los países de nuestro entorno en francia en alemania

en todos nos dice

plan b para la vuelta de navidades bueno yo creo que le podemos llamar equis

es que desde la vuelta de navidades todos los gobiernos y el gobierno vasco también han estado adoptando decisiones precisamente para bajar

pero se han estado adoptando todas esas medidas medidas que se nos han ido comunicando en la comisión de salud semanalmente y que conocen y esta semana llevamos por ejemplo ya cuatro días por debajo del millar de casos diarios la tasa acumulada de ayer era de cuatrocientos veinticuatro por cien mil habitantes

en los datos hospitalarios pero coincido en algo con lo que ha señalado la señora ubera porque es que coincidimos todos

la comisión estamos muy lejos del objetivo y las medidas se siguen implementando para conseguir objetivo tenemos que seguir con prudencia continuar con las medidas restrictivas y tenemos que seguir apelando también a la responsabilidad personal de los ciudadanos y ciudadanas yo creo que ese es un mensaje muy potente que nunca tenemos que olvidar en la iniciativa o en la transacción que ahora se recoge yo no sé si eso

el plan b al que hace referencia eh bildu en su

y lo hemos analizado claro aquí hay quienes nos dicen no no va a salir adelante porque el gobierno va a aplicar su mayoría no no va a salir adelante porque los partidos que sostenemos al gobierno partido socialista y partido nacionalista vasco

o ya se están haciendo o incluso algunas no es que no sea necesario hacerlas es que podrían llegar a ser hasta contraproducentes hacerlas me voy a explicar cuando se habla de las entidades de colaboración y se habla de la necesidad de colaborar con ellas para el testeo pues eso es lo que precisamente

tal y como se responde por parte del departamento en las respuestas a las solicitudes de información documentada y preguntas por escrito

iniciativa me llama un poco la atención no se habla de

sí sí y fíjese si estamos de acuerdo que precisamente partido socialista y partido nacionalista vasco hace una semana votaron a favor de unos presupuestos que aumentaban

la capacidad de gasto de investigación entre otros en estos tres institutos claro es que hoy nos dicen quienes no han aprobado esa subida del siete por ciento que hay que destinar más dinero eso es así

respecto a reforzar el equipo de coordinación para que todos los equipos actúen de forma coordinada pues estamos de acuerdo

desde el principio con respecto a la cuestión de la planificación no voy a entrar en la vacunación porque ya hemos tenido un punto entero en el que hemos hablado de ello

y respecto a la red de rastreo pues he explicado la última vez ayer mismo

que se está usando y se ha explicado en numerosas ocasiones cómo se han incorporado nuevas personas a los equipos de rastreo y luego con respecto

más dudas porque me plantea evidentemente dudas que es con el tema de los cribados de la lectura de lo que se nos plantea

aclaración que estamos hablando digamos de una actuación de política masiva de cribados y claro

pero en función de criterios epidemiológicos muy concretos y por cierto ninguno de ellos ninguno de esos criterios está ligado a adelantarse a nada

tal vez debemos hacer caso por ejemplo a lo que se recoge en la estrategia de detección precoz vigilancia y control del covid diecinueve

en determinadas situaciones muy concretas en ningún caso generalizadas relacionadas con una alta transmisión de un área geográfica también concreta o en población diana y cuando se dan esas condiciones

ayer mismo lo explicó la consejera y de hecho incluso por solicitud de información documentada tenemos la respuesta relativa a la secuenciación de las muestras

cribados por tanto cuando se afirma que aquí los diferentes grupos que apoyamos al gobierno vamos a votar que no no se puede trasladar la idea con esto acabo de que lo hacemos porque nos da la gana no

creemos que la enmienda como es el caso que nosotros planteamos responde más claramente a la realidad que estamos viviendo nada más y muchas gracias eskerrik asko

a su larga justificación de esta pnl comienza expresando algo que es muy común y repetitivo

como prácticamente todos los países del mundo si euskadi fuera una isla tuviera una cantidad de recursos económicos enormes que le permiten resistir durante seis meses cerrados a cal y canto en todas sus actividades sociales y económicas y la ciudadanía fuera además soporífera y lo soporta pues en ese tiempo lo lograríamos aunque en el mismo australia pegado a nueva zelanda país bloqueado por todos los lados hoy me he enterado hay cuarenta australianos que llevan un año viviendo fuera de australia y no les dejan entrar bien hace una semana ha surgido un caso de covid en melbourne

para todo iban supuestamente por delante pero tuvieron que volver a ponerse por detrás del virus por lo menos durante esta semana y ellos mantienen

pero es que una pandemia de un nuevo virus es lo que tiene

bien por un contagio masivo o más preferiblemente por una vacunación masiva el virus se mueve con enorme facilidad y se adapta para lograr el mayor beneficio como cualquier ser vivo

lo más probable es que modifique su genética para provocar menos

le va en ello a cambio mutará para debilitar su ataque pero para contagiar con más facilidad y llegar a más hospedadores variedad británica el virus no es malo o no tiene conciencia de serlo para nada

por lo que es mucho más rápido que el ser humano que sí vivimos mucho más tiempo que el virus pero a cambio somos mucho más estables genéticamente y con muchísima menos capacidad de adaptación

hace meses se le pedía al gobierno vasco que imitara a portugal o a alemania no sé si lo recuerdan

ahora esas voces se han callado porque han visto las enormes subidas de casos en esos países países que parecía empezaban a adelantar al virus y de repente volvían a tambalearse poniéndose detrás y es que

es como ir conduciendo por una estrecha carretera detrás de un conductor borracho

solo hay dos posibilidades de salvarlo pararte en el arcén y esperar a que se vaya

y adelantar el primero es el confinamiento el segundo es la vacuna

es muy difícil sin arriesgar demasiadas cosas hecha esta introducción pasaré a intentar explicar los puntos de la proposición lo que usted

pero eso sí que esta se base fundamentalmente en el cribado a ver planificación tiene pero no puede basarse en el cribado o solicita una estrategia o solicita cribados

porque los cribados tienen su sentido y justificación en función de criterios epidemiológicos muy concretos y ninguno de ellos está

los cribados son para localizar personas contagiadas que ignoran que lo están y de esta manera sacarlos cuanto antes de la calle pero no es para nada la base de una estrategia sanitaria pregúntele con más concreción a su epidemiólogo o epidemióloga de cabecera

que no se sabe de dónde vienen las redes de rastreo se dedican a perseguir al virus a partir de contactos estrechos de personas y las van siguiendo

los rastreadores siguen esos hilos y van localizando positivos a veces esos hilos se pierden y aparecen casos nuevos no conexos

y no todos los cribados tienen como resultado la localización de muchos positivos de hecho los epidemiólogos consideran que un cribado ha sido exitoso cuando por lo menos un uno por ciento de los analizados han dado positivo por cierto

una empresa un pueblo una comarca una ikastola hecho hoy ni garantiza ni evita que mañana mismo una vía de contagio

entre otras cosas porque un cribado no es una vacuna no podemos confundirlo ya respecto a los otros puntos

fomento prevención cuidado de la salud para desarrollar con efectividad la estrategia de testeo seguimiento y vigilancia epidemiológica

y sus cinco centros de investigación que por cierto son muy prestigiosos por otro lado pide reforzar el equipo de coordinación de la estrategia para hacer frente a la pandemia para que todos los equipos actúen de forma coordinada y ganen en efectividad en su actividad diaria qué es lo que ha hecho el departamento desde el comienzo de la pandemia

aparte de usted el propio gobierno vasco y especialmente el departamento de salud son conscientes que eso es la prioridad

a la estrategia de campañas de vacunación si ha estado atenta que estoy seguro que sí al anterior debate que hemos tenido pues lo doy por

la plantilla de rastreo a la que también se refieren se ha seguido reforzado en función de las necesidades que han surgido hoy tiene más de quinientos veinte profesionales lo que supone

luego el ritmo hemos mantenido el porcentaje de positivos identificados por contacto se mantiene

el rastreo ampliado retrorrastreo para ir más allá de tres días se va hasta siete o diez días

todo incorporando nuevos técnicos especialistas los laboratorios han modificado sus procesos y en estos momentos los laboratorios de microbiología de la red de diagnóstico biológico de osakidetza trabajan mañana tarde sábados y domingos respecto a otra vez la vacunación pero los equipos de vacunación en estos momentos el departamento

equipos de vacunación mucho más generosos que las vacunas que realmente están llegando y para terminar en lo que se refiere a reforzar la secuenciación otra palabra que ha surgido en todo este marasmo de esta pandemia

la secuenciación es solo una de ellas y se ha reforzado para todo eso las técnicas plantillas técnicas y auxiliares

lo que supone que siendo honestos debemos reconocerlo y por tanto la hemos enmendado en el sentido de pedirle al gobierno que siga haciendo lo que viene haciendo

profundizando cuando por los datos de los que ellos disponen así lo entiendan lo que se está haciendo para saber cómo va y funciona la epidemia es lo correcto

cada vez que se dispara la epidemia se corrige a ustedes les parecerá poco nosotros creemos que es lo que hay que hacer porque entendemos que el gobierno lo viene haciendo bien y corrigiendo el rumbo en función de los datos que van recogiendo y que analizan diferentes expertos

epidemiólogos que por cierto al menos los del gobierno tienen para su formación algo más que un cursillo y que no lo duden saben de este asunto no solo más que ustedes y yo

el mundo en euskadi incluidos los magistrados y son ellos los que marcan la pauta de las diferentes actuaciones que hay que hacer y ellos me consta no están pensando en beneficiar a unos y a otras o en perjudicarlos ellos y ellas epidemiólogos y epidemiólogas andan

intentando permanentemente que no nos estrellemos a partir de ahí y por eso el último punto de nuestra enmienda sus propuestas exclusivamente epidemiológicas hay que adaptarlas

al necesario equilibrio entre medidas de control epidemiológico y la necesaria recuperación de una actividad social normalizada siempre prevaleciendo la salud

aquí de la manera más didáctica que he podido un parlamentario que en el fondo no dejamos de ser más que un ciudadano

ese que se empeña en darnos clases de democracia a quienes hemos sufrido la violencia que amparan nos trae una proposición casi calcada a la moción que acaba de presentar vox

sí democracia representativa ustedes viven de crear enemigos y de perseguirlos da igual quien caiga sin importarles lo que llamarían efectos colaterales qué les hace a ustedes creer que tienen más legitimidad que vox para exigir a este gobierno un protocolo preciso de vacunación

no señores de bildu este parlamento les queda muy grande ustedes saben mucho de violencia y muy poquito de democracia

ustedes saben utilizar cualquier tipo de medio para imponer sus ideas y para callar aquellas que no les gustan

y voy a leer literalmente seguir vigilando y tomando decisiones para el control de la pandemia

obviando sus pésimos resultados y su pésima gestión sigo leyendo generalizar la administración de vacunas siguiendo los protocolos

manchada por esta crisis sanitaria económica y social pero es más sigo leyendo tener presente

entre las medidas de control y la reactivación económica cómo nos dicen ustedes esto

la ruina a la que han condenado a miles de empresarios autónomos y trabajadores

un grupo de políticos amigo de terroristas intentan lavar su imagen con un cordón sanitario que entre otros ha padecido la asociación española de lucha contra el cáncer y que hoy nos cuenta que está preocupado por las consecuencias del covid diecinueve en nuestra sociedad señores de bildu

a vox también forma parte de esta sociedad y dos partidos que defienden sin escrúpulos la inoperancia del gobierno que soportan que aquí nos plantean seguir con lo que están haciendo a pesar de los fallecimientos de la saturación de recursos sanitarios

ustedes señores del gobierno siguen jugando con la vida y el futuro de muchas personas además personas que son votantes de su partido votantes de vox votantes de pp

y ven su incapacidad además nos afectan a todos es un punto de encuentro entre todos y ustedes

en su lucha de poderes anteponiendo el bienestar a la salud de nuestra sociedad eskerrik asko martínez andrea

bakarrik bi eremutan mugatzen da retrorastreoa encuentros sociales en torno a la hostelería

se nos dice una serie de cosas sobre que pedimos cosas que el gobierno ya está haciendo

márgenes de mejora y que el gobierno considera que hay margen de mejora y que va mejorando sobre la marcha y a la vez

del gobierno y de los grupos que sostienen al gobierno se apela al trabajo en común se apela

en una situación complicada ante un virus que como usted suele decir

instrucciones y cuando la oposición plantea cosas en términos propositivos y que además según ustedes

del propio gobierno de avanzar de mejorar de buscar los márgenes de mejora pues ni siquiera se sientan a hablar

no comprendemos y creo que como he dicho antes esta era una iniciativa sobre la que se podía hablar y sobre la que efectivamente antes

acuerdos en términos de margen de mejora del gobierno sobre cuestiones que el gobierno consideraba que de alguna manera ya estaba haciendo por eso no lo entiendo

parlamentaria de vox la que me explique la definición de un término es verdad que yo no puedo conocer la definición exacta del término esperpento pero como la mayoría de la gente de la calle pues sí sé que es un término pues negativo lo he mirado en el diccionario

la segunda dice género literario que se caracteriza por la presentación de una realidad

interesante que nosotros se va a aprobar se va a someter a votación

y lamento que el gobierno una vez más solo se centre en su enmienda a la totalidad y

propuestas que están en este acuerdo que creemos que incide además

hay que reforzar que sin ninguna duda son muchas y yo lamento

adopten esta actitud de cierta autocomplacencia y de no considerar que todo lo que se hace está bien pues no

presidenta por dónde empezar hablar con gran humildad estoy de acuerdo señora ubera y de hecho le aseguro que

la actitud de mi grupo y mi actitud es esa incluso fíjese señora ubera siendo consciente de que jamás llevo toda la verdad jamás que creo que es lo que igual algunos cuando se suben aquí se olvidan que muy posiblemente

pero el problema es venir aquí a intentar descalificar lo que se está haciendo e incluso

toda la información que se tiene para plantear que todo está siendo un caos y yo es que identifico claramente esa actitud esa actitud está existiendo en estos momentos hay quienes han decidido

para sumar a la idea de que todo es un caos yo no he dicho que el gobierno lo haga todo bien es más he dicho lo contrario fíjese

que tiene márgenes de mejora este y cualquiera y he dicho algo que también es evidente y es que como sabe y es consciente de que hay márgenes de mejora los explora y toma esas decisiones de mejora lo que pasa es que ustedes intentan trasladar que eso no es así pero no es verdad

jo tendríamos que ir a la hemeroteca y a los diarios de sesiones

que eso es debido a la inoperancia obviando que estamos cambiando constantemente las estrategias porque vamos

al bicho vamos conociendo poco a poco al bicho y es así esa es la realidad

o insinuar porque es peor no se dice se insinúa ni siquiera se tiene la gallardía de decirlo abiertamente

porque el gobierno no quiere sabiendo que es porque no se dan las circunstancias para hacerlo de otra manera como por ejemplo

como es que hay gente que no sabe cuándo le toca vacunarse claro

ni aquí ni en ningún país del mundo existe un calendario donde diga que el doce de junio

en ninguno y decir que eso se podría hacer es generar falsas expectativas y es seguir pegando seguir pegando al avispero y luego decir no es que las abejas están picando claro

yo le he dicho antes yo lo único que exijo aquí es responsabilidad

que los grupos no compartamos lo que dicen otros grupos lo entiendo

y proyectos diferentes lo entiendo pero también

en los que hacemos frente a situaciones tan críticas como la que estamos viviendo

lanzar a la ciudadanía es apartar un poco algunas actitudes partidistas

para hacer frente a la peor de las pandemias

jamás yo no frivolizo

en el caso concreto hablo de los cribados les pongo las dudas y es que le he dicho además de dónde saco esas dudas le he dicho del documento exacto y del instituto carlos tercero que no recomienda en ningún caso esa extensión indiscriminada de cribados creo que es argumentar

dotar de más recursos a institutos de investigación y luego votar en contra de ampliar del siete por ciento de los presupuestos la semana pasada creo que estoy dando datos tendremos diferentes formas de darlos pero yo les puedo asegurar

y para terminar porque tendría bastante dos menciones claro que hay márgenes de mejora y claro que se acuerda con los grupos señor hernández claro pero claro yo también le podría decir que a veces me da la sensación de que para qué acuerdo porque hace menos de

una iniciativa respecto a incorporar a personas que ayuden precisamente en la

y hoy nos vuelven a traer algo parecido es que

se llega a acuerdos y para qué y por último el esperpento a mí el cuerpo me pide dedicarle un monográfico

pero le diré que actitudes como la suya y volver a repetir algo que incluso la señora garrido se lo ha dicho que los protocolos existen que las estrategias existen mire luego si quiere le doy hasta yo la carpeta pero la puede sacar de internet es que ni ha buscado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

eskerrik asko mahaiburu andrea no sé usted señora ubera se ha referido a la frivolidad

porque yo nunca he intentado ser frívolo de verdad yo para mí hay un problema cuando se viene una pnl de este tipo en estas materias que hablamos de pcr de cribados de secuenciaciones

lo están incorporando de una especie de mito semántico pero

y le gustará más o menos mis metáforas sobre el coche detrás de un borracho pero es una manera didáctica de intentar explicar si le parece frivolidad pues a lo mejor cambio el discurso o a lo mejor usted no me escucha hay dos cosas pero

es decir que hombre una vez más venimos a hablar de esto porque este es un tema muy importante porque lo hace mal no no esto esto viene aquí porque lo traen ustedes porque se empeñan en traerlo

claro también eso de decir sin más convivir con el virus es una mentira es lo que hace todo el mundo

a lo mejor menos nueva zelanda así visto que ya os explicado que en nueva zelanda es muy distinto lo que hace nueva zelanda es vivir arrinconado escondido

a ver si eso no es convivir con el virus o con el posible problema del virus

no se puede hacer esa frase como diciendo ya está eso es lo peor que no es lo que ocurre cuando aparece un virus

cerrando unas cosas abriendo otro poquito por aquí por allá

y luego también epidemiólogos hay de todo tipo y condición yo creo que en la responsabilidad de ellos que son más expertos que los demás

también está medir mucho lo que se dice hoy hoy veía en primera página de un periódico una microbióloga que es muy buena microbióloga

no es materia de ella ni la del medio de comunicación abundar en el confusionismo que tiene esta sociedad por favor un poco de responsabilidad por parte de todos

también reclamen eso y no se aprovechen de lo que se dice sino que reclamen esa responsabilidad por parte de todos señora

esa es de la legislatura pasada y ya está amortizada en unas elecciones este grupo

también le voy a decir una cosa en la comisión pasada todos los grupos recordaron

que la fiscalía lo ha sobreseído hay que ser para cuando se mete la justicia con el gobierno sí recordarlo pero cuando la saca también deberían recordarlo eso es honestidad

y es curioso que ustedes apoyen esta transacción tan entusiásticamente cuando los grupos

de medidas más duras cuando ustedes llevan militando meses sobre que hay que abrir los bares las discotecas y todo me remito a su compañero carmelo barrio en la última tertulia de radio euskadi

barrio jauna y nos reprochan que

en la transacción cómo entienden ustedes la acción política yo entiendo que si unos grupos están acosando al gobierno

con una pnl de reprobación a la consejera llamándole mentirosa

que el grupo que apoya al gobierno le va a dejar sola al gobierno y a la consejera transaccionando materias de sanidad

entiendo con coherencia la acción política con coherencia

estoy diciendo que no se puede sacudir con una mano y abrazar con la otra no se puede o yo lo entiendo así y yo soy el que en estos momentos lleva estas materias y por último señora garrido

tengo tres tres patologías graves susceptibles del covid puedo estar preocupado en la calle cuidándome pero yo sé que el gobierno salud

el día que me corresponda puedo internamente pensar

que está gritando en los medios de comunicación que ellos ya son de primera línea de no sé qué y yo estaré pensado que seguramente yo soy antes pero lo pienso yo

rápidamente señor rico es curioso que usted tenga los protocolos de vacunación cuando llevamos toda la oposición pidiéndolos prácticamente toda la mañana

y en segundo lugar señor hernández ha sido usted muy habilidoso a la hora de buscar en el diccionario la palabra esperpento o esperpéntico efectivamente tiene dos definiciones persona que destaca por su fealdad desaliño o apariencia dígame señor hernández si esta definición no se ajusta a su jefe echenique arengando a los antifascistas a quemar ciudades a destrozar comercios y a agredir a policías y en segundo lugar efectivamente es un género literario que se caracteriza por la presentación de una realidad deformada y grotesca

como son sus partidos señores de podemos que dicen sí o no a las iniciativas presentadas según quién las proponga esto es un esperpento señor hernández y no vox en este parlamento hay que usar las palabras con rigor señor hernández

privada en la que usted ha estudiado no le hayan enseñado esto muchas gracias eskerrik asko martínez andrea